euskadirentzat marko juridiko politiko berri bat lortzeko konpromisoa trasladaba el lehendakari a este parlamento cinco reflexiones

que suponen cinco compromisos personales con el mismo ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito de la unión europea analizar el reconocimiento de euskadi como nación y la consideración de los derechos históricos como poder constituyente ofrecer vías de ampliación al autogobierno y avanzar hacia una nuevo estatus

y disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del estado la unión europea y la acción internacional y todo ello basado en dos principios pacto y democracia pacto y democracia lehendakari dos principios fundamentales reiterados por usted desde el primer día y que hoy ante la situación que vive cataluña cobran todo su valor

ante la falta de reconocimiento y respeto a las realidades nacionales ante lo que parece

su propuesta nuestra propuesta es pacto

pacto y democracia que suponen el reconocimiento de la realidad nacional propia de euskadi o de cataluña y la asunción de la plurinacionalidad del estado pacto y democracia que requieren afrontar con una visión constructiva la redistribución de la soberanía del estado y favorecer

pacto y democracia que se contempla como principio en el programa de su gobierno

más y mejor autogobierno comenzando por asentar la base que supone la defensa y reclamación del autogobierno reconocido más en concreto la puesta en marcha de mecanismos políticos jurídicos e institucionales para reclamar la culminación de las transferencias pendientes

la vía vasca se asienta sobre esta base firme de la reclamación del autogobierno reconocido para avanzar

esa es la vía vasca lehendakari su propuesta de construcción nacional y social de euskadi que es también nuestra propuesta egunean eguneango

euskal erakundeen babesa gehitu eta babesa gizarte osoari zabaldu tal y como usted ha comentado

demanda aunar fuerzas y actuar desde el respeto y el reconocimiento mutuo

y social progresiva de euskadi este es el espíritu esencial del autogobierno asumir este principio de realidad reconocer

es algo que está brillando por su ausencia en estos momentos también a mí me ha preocupado la contumacia en construir una realidad paralela

hacerlo desde los poderes del estado con la sensación de que no pasa nada

hacerlo contraviniendo incluso las solemnes declaraciones en las que se afirma con rotundidad que la ley está por encima de todo eso sí con la excepción de aquellas leyes como el estatuto de gernika que se mantienen sin cumplir en

realidad paralela de no reconocer la necesidad de garantizar un sistema de relación bilateral

que no ha funcionado con las garantías debidas errealismoa elkarrizketa eta aldebikotasuna da bidea bide bakarra

y convirtamos este acuerdo en un ejemplo de efectividad práctica de las vías dialogadas y acordadas no hay otra vía

pacto y democracia siempre estamos a tiempo de dejar atrás la confrontación e iniciar el diálogo hoy podríamos salir de esta cámara

compromiso que se debería materializar con la aprobación unánime del informe de transferencias presentado un paso necesario conveniente positivo

la concordia y el bienestar de la ciudadanía eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

la base del problema es que antes de poner en cuestión la supuesta unidad del estado español y de españa el estado español ha dado por buena cualquier opción incluida la violencia y lo han disfrazado

y nuestra propuesta señora iriarte responde al deseo de diálogo acuerdo

y si fuera requerido mediación forma parte de una corriente internacional y está siendo expresada por representantes políticos de cataluña

y asimismo son muchas las voces en el estado español que la demandan

tan cierto es el arraigo social del principio del derecho a decidir como la defensa también mayoritaria de una solución pactada lo reitero

la realidad al completo por mi parte no pienso sentarme no lo estoy

mucho menos a alentarlo prefiero empeñarme en buscar vías de solución

y la voluntad de acuerdo tanto en mis intervenciones públicas como en las que no lo son eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

egin beharrekoa en todo caso la relación de euskadi con quebec y canadá tiene una dimensión por lo que es la referencia al próximo viaje que trasciende al ámbito político y me interesa decirlo porque mantenemos relaciones con medio ambiente

donde planteamos este encuentro precisamente este encuentro nace de aquel encuentro

o lo que son las relaciones en desarrollo económico e innovación el programa horizon dos mil veinte en cultura y patrimonio en el marco de la unesco

desde el primer día desde los años noventa y cinco noventa y ocho dos mil en adelante desde el primer día esta ley establece las condiciones en las que el gobierno abriría negociaciones que podrían conducir a la independencia de una de sus provincias tras la celebración de un referéndum en la misma el tribunal supremo de canadá

un conflicto territorial el dictamen estableció que la aspiración a la independencia es legítima y debe ser atendida tratada y resuelta por el estado debe hacerse a través del diálogo inspirado en el deber de negociar de buena fe

no está predeterminado el tribunal supremo estableció que el proceso debe respetar la legalidad y que si concluye en una decisión de independencia pactada

una reforma constitucional reglada que la haga posible estas son las pautas marcadas en canadá para abordar de forma democrática y constitucional

en euskadi estamos recorriendo nuestra propia vía y la ley de claridad sigue siendo un modelo inspirador que nos interesa conocer de primera mano pero también

a los grupos parlamentarios en la ponencia de autogobierno en la responsabilidad que tiene la ponencia de autogobierno eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

conocemos el trabajo que tiene que hacer la ponencia de autogobierno y ahí estamos pero como veis una propuesta por parte del propio lehendakari en este sentido como ejemplo pues queríamos saber el impulso que le podía también por

que existen dentro del gobierno nos genera una cierta preocupación los límites que puedan suponer la actual coalición de gobierno

sentido porque sabemos que el partido socialista de euskadi no ha movido su postura en lo que denominamos el derecho a decidir

y que a la vista de los acontecimientos de las últimas semanas este mismo partido reconoce a mariano rajoy como interlocutor principal para abordar la cuestión catalana cosa que nosotros consideramos un error ni si quiera

el grave y preocupante discurso del rey un discurso que estuvo al servicio del partido popular baina zuen gobernu akordioan autogobernuari buruzko asuntoak

balio zaigun itun bat tal y como dijimos en el momento de presentar nuestra propuesta sobre autogobierno nuestra apuesta es por un pacto de claridad un pacto entre los partidos vascos que sirva para la consecución de las herramientas legales necesarias para desarrollar

y hoy más que nunca también la catalana demanda un pacto que de forma similar a la ley de claridad canadiense

con mayorías claras preguntas claras mayorías cualificadas

de un proceso este pacto con esos contenidos lo propondríamos también que se remitiera al congreso de los diputados instando al aprobar la suerte de ley de claridad que valdría para euskadi

del estado siendo pioneros y ejemplo a la hora de proponer soluciones no solo para euskadi sino también para cataluña o el resto del estado beraz ikusita hau eta ikusita

las bases de la ley de claridad canadiense son de aplicación en nuestro caso señor martínez repito evitar el conflicto la independencia como aspiración legítima diálogo negociar de buena fe reforma constitucional que haga posible pactar la independencia tras la celebración de un referéndum

que esta aspiración es legítima y existe tanto en cataluña como en euskadi y el gobierno español debería abrir un diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo nuestro camino

y es a la ponencia de autogobierno a la que corresponde escribir el camino

negociar un pacto con el estado y lograr la ratificación de la sociedad vasca haremos lo posible para avanzar por esta vía beraz kanadako argitasun legea eredu bat da

poner el foco en las emergencias de la ciudadanía de euskadi en concreto de las emergencias de quienes aspiran a disfrutar de su derecho a disponer de una vivienda que puedan

de otros lugares concretamente de cataluña que ha estado presente en las emergencias de otros grupos que nos han precedido

por los derechos políticos y civiles que han puesto en peligro la arrogancia del gobierno catalán y la incapacidad del gobierno de españa están en peligro esos derechos y está en peligro la convivencia por ello los socialistas vascos reiteramos hoy nuestro compromiso con el pacto de país

hace casi un año para que los diferentes vivamos juntos y atendamos las necesidades reales de los vascos y vascas y de los retos a los que se enfrenta nuestra

que comparta ese compromiso y os pedimos no lo podemos evitar que lo mimen que cuiden esa oportunidad de seguir garantizando esa convivencia plural y que la podamos legar a las próximas generaciones creemos que es la mejor de las herencias que puede dejar este gobierno

que creo que compartimos es que hemos sido capaces de estar a la altura de hacer lo que otros han sido incapaces de hacer ofrecer certidumbres y respuestas a la ciudadanía en algunas intervenciones públicas y entrevistas periodísticas el consejero

y vivienda ha manifestado su preocupación por el hecho de que la aplicación del actual sistema de varemos para establecer el acceso a la adjudicación de viviendas de alquiler social

además y en otras cuestiones los actuales baremos

el acceso de los jóvenes a la vivienda de alquiler y la satisfacción de los titulares del derecho subjetivo a la vivienda por eso señor consejero le pregunto qué criterios está pensando introducir su departamento a la hora de la adjudicación de viviendas en alquiler social eskerrik asko

la menor duda de que mi mayor prioridad es trabajar para garantizar la convivencia un país en el que quepamos todos y todas

ni excluida nada tendría sentido si nos dejáramos confundir por cantos de sirenas que quieren conducir

pero tengo confianza en que nuestro piloto y la tripulación

y en consecuencia el pasaje y la carga

y llegarán a puerto seguro dicho esto

convendrá conmigo en que la política de vivienda es un eje fundamental

condiciona en muchas ocasiones el acceso a otros derechos por eso es tan importante la apuesta que hemos hecho en euskadi por garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en alquiler

no sobran precisamente es de justicia que su asignación se realice de acuerdo a criterios objetivos basados fundamentalmente en los ingresos y la situación familiar pero como indicaba en su pregunta es cierto que a veces las simple adjudicación en base a estos criterio

con el modelo social integrado dentro de la diversidad a que creo que debemos de aspirar un modelo basado en la combinación de tipologías de viviendas y colectivos humanos diversos en un mismo entorno edificado

establece efectivamente que las viviendas públicas y los alojamientos dotacionales se adjudicarán entre los solicitantes según

la renta disponible el número de miembros de la unidad familiar y también la antigüedad en la demanda pero esta misma ley contempla la posibilidad de fijar

de manera que se garantice la cohesión social a través de la mezcla y de la diversidad

las estamos debatiendo en el marco de elaboración del nuevo plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

y entidades tras su contraste y debate se recogerán en el futuro decreto de inscripción y adjudicación del servicio vasco de vivienda etxebide que sustituirá

de dos mil doce sí le puedo adelantar que los y las jóvenes serán un colectivo preferente y ello porque queremos cumplir con este compromiso recogido en nuestro programa de gobierno en política de vivienda y también serán preferentes los y las titulares

de los programas sociales destinados a favorecer la inclusión porque lo mismo que si no garantizásemos

si el resultado no es un modelo integrado de sociedad muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko arriola jauna gracias su apuesta por los jóvenes de este país gracias por su disposición

contando con los agentes sociales de este país como está haciendo con

sobre el decreto el derecho subjetivo a la vivienda le agradezco especialmente que como socialista aporte a ese gobierno ese punto de equilibrio y que además comparta con el gobierno esa máxima

en resolver los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de este país y no en generar más problemas estoy convencido que los ciudadanos y ciudadanas de euskadi

alonso jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari
yo le preguntaba hoy por estabilidad en el contexto en el que estamos viviendo y yo

lo que está ocurriendo en cataluña cómo en esa comunidad se ha quebrado la convivencia cómo los

del derecho al margen de las leyes han construido una legalidad paralela y las consecuencias que eso está teniendo y últimamente estamos viendo las de tipo económico

y por tanto todo esto supone una amenaza contra nuestras libertades un desafío contra nuestra constitución pone en riesgo la recuperación económica pone en riesgo el bienestar social no solamente en cataluña sino en el conjunto de españa se sitúa al margen de una vocación en europa

para que no hubiera fronteras pero nació también para que no se tuviera que cambiar nació para viviéramos en una comunidad de derecho por encima de que unos puedan imponer la voluntad sobre los otros yo estoy preocupado yo creo que todo eso debe ser rechazado

una fecha de aquí al lunes donde algunos que han llegado hasta el borde del abismo amenazan con arrojarse a él y con arrastrar detrás de ellos todos estos bienes que debemos proteger

yo no las comparto y creo que además hay riesgo de abrir caminos inciertos

es su obligación que actúe con responsabilidad

a mí no me han gustado algunos posicionamientos de su partido político en estos días a mí no me gustó que la semana pasada en este parlamento se diera aliento y se aprobara una declaración

yo tampoco comparto cómo informa su televisión pública yo no comparto que su partido secunde manifestaciones que jalean también esa actuación al margen del derecho y al margen de la sensatez yo quiero que usted lidere y que se pueda rectificar esa posición y que no se aliente yo le pregunto a usted y yo sé que usted es responsable no le parece que el primer paso

que se lo hemos de pedir que renuncien también a situarse al margen del derecho y al margen de las normas que rigen en españa

yo le pido que usted lo lidere también desde euskadi y lo lidere a sus compañeros catalanes que renuncien a la declaración unilateral de independencia
el lunes que rectifiquen y que utilicen un camino distinto eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

por el bienestar de los catalanes y catalanas y por su desarrollo futuro según el respeto que tengo a lo que sea la decisión de todos los catalanes y catalanas

pero lo sabe usted muy bien también en todo caso su pregunta es por la estabilidad política y yo le digo que mi apuesta es

y es permanente y lo va a seguir siendo lo hemos demostrado desde el primer día de

conscientes de nuestra posición de minoría sí pero también por vocación y por voluntad

hemos buscado por convicción la estabilidad y el acuerdo para afrontar los retos del país en este sentido hemos reconocido los acuerdos positivos en la comisión mixta del concierto y en la junta de seguridad satisface a ambas partes

y refuerzan la bilateralidad con garantías y son acuerdos y me permito recordárselos señor alonso que pueden servir de modelo

una ley incumplida por los diferentes gobiernos españoles desde hace treinta y siete años y es una buena oportunidad para predicar con el ejemplo y demostrar que quien dice defender el estatuto lo completa y quien afirma defender la ley la cumple cumplir el estatuto también es invertir en estabilidad

entre los espacios en los que hablamos y comprendo también sus esfuerzos y lo comprendo de verdad ahora le voy a contestar a lo que usted me plantea

que de cada cien euros que recauda pues gasta noventa y tres digamos que

o que tenemos el doble de financiación per cápita que otras comunidades en españa por tanto esa es la realidad y esto lo tenemos que cuidar

y no mantener una posición clara respecto a lo que ocurre en cataluña y cerrar ese camino hacia esa independencia

que en este momento hay que retirar el apoyo a un camino que nos lleva a la locura lo creo sinceramente creo que es importante su obligación es evitar

lo que está pasando en cataluña y que la convivencia aquí salte por los aires o que vivamos al margen del derecho gracias eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea pues señor alonso a mí me interesa hablar sí de cataluña pero me interesa también hablar de lo nuestro y su pregunta

y de lo nuestro mire yo coincido en la importancia de la estabilidad política institucional para ofrecer un horizonte de continuidad al crecimiento de nuestro país al que usted ha hecho mención

yo mantengo todo lo dicho desde el día veintinueve de agosto hasta hoy

que vaya a las fuentes y no a los titulares de prensa como muchas veces

claramente textualmente literalmente todas mis declaraciones son públicas y están publicadas por lo tanto ratifico todo lo que he dicho palabra a palabra y con el sentido de lo he dicho y me

ahora bien estabilidad no significa dejar de afrontar los problemas y precisamente por coherencia voy a seguir manteniendo los principios y propuestas que permitan superar las situaciones de incertidumbre como las que estamos viviendo mi posición es en este caso también y en relación a lo nuestro transparente y reiterada reconocer la existencia de las realidades nacionales vasca y catalana

y avanzar en el reconocimiento efectivo de un estado plurinacional asumir la responsabilidad afrontar los problemas de naturaleza política y ofrecer soluciones políticas apostar por la vía del diálogo la mediación y el acuerdo frente a las decisiones unilaterales o la imposición

afrontar con una visión constructiva la redistribución de la soberanía del estado y favorecer la defensa de la identidad de sus respectivos pueblos en el marco de la unión europea

y no dejar su materialización al arbitrio y capricho de una de las partes reconocer

asumir el diálogo y la negociación con voluntad de acuerdo y pacto ratificar la solución por vías exclusivamente pacíficas y democráticas

gracias señora presidenta egun on guztioi lehendakari consejeros señorías señor lehendakari

le parece menor la pregunta que hoy le planteo para nosotros para nuestro grupo no es menor es grave pero se la planteo

fundamentales en primer lugar porque usted es el máximo y último responsable de todas las decisiones que se toman en aquellas instituciones que dependen

y el segundo motivo es que preguntárselo al consejero correspondiente al consejero del que depende e i te be el consejero de cultura

señor urkullu me producía vergüenza aunque parece que esa vergüenza que me produce a mí que nos produce a nuestro grupo a usted y a su gobierno

ustedes serían los primeros que estuviesen clamando al cielo pero aquí parece que este tipo de anomalías familiares son normales quiero que vaya por delante dos cuestiones una

que era porque era una mujer si hubiera sido el marido de la señora

y la segunda cuestión que no pongo en duda en absoluto la capacidad profesional

pero lo que quiero preguntarle señor lehendakari es si le parece a usted una decisión objetiva que la pareja del consejero de cultura el señor a la que insisto no cuestionamos profesionalmente sea la editora de los informativos cree realmente que entre todos los profesionales que existen en etb que entre todos los trabajadores y todas las trabajadoras que en este momento

la señora bolinaga era la más adecuada en este momento

para ese puesto le parece no sé si ético pero desde luego estético que la pareja del consejero de cultura del que tiene que responder

sea la que decida qué entra en los informativos y cómo se dan las noticias de los informativos espero su

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos como ha empezado usted por una consideración general en relación con el

aparato público dependiente autonómico voy a empezar también yo por ahí

está dotado de personalidad jurídica como usted bien sabe y está creado por este parlamento del que usted forma parte su directora general está nombrada por este parlamento

está nombrada por la directora general de e i te be con arreglo a criterios de estricta profesionalidad tal y como aparece recogido en la ley y fue inmediatamente comunicado a la comisión

la editora su nombramiento la editora de informativos forma parte del ámbito de responsabilidad de la directora de informativos y su nombramiento fue comunicado inmediatamente también a la comisión

del ente del que usted forma parte el día dieciocho de julio y en su presencia cuando estaba usted presente usted participa regularmente además

de la comisión parlamentaria de seguimiento y control de e i te be

organizativos o de personal el gobierno usted lo sabe perfectamente no gestiona e i te be que goza de autonomía de gestión absoluta expresamente reconocida en la ley de creación ni nombra ni cesa

de los integrantes de su plantilla y por supuesto ni nombra ni cesa a las personas que integran sus equipos informativos por tanto

ni opina ni tiene criterio ni opinión sobre la oportunidad sobre la validez

gracias de nuevo señora presidenta

de sorprenderse porque dado que no estaba el consejero de cultura

el encargo a usted señor erkoreka mire no lo comunicó

parlamentaria en ese consejo de administración consejero no lo comunicó y no me ha contestado

se esconden en que no tienen criterio en que no tienen criterio mire es que el criterio de verdad si hubiera sido

mire a quien no beneficia esta decisión es

le resta credibilidad da la imagen de un corralito

hecha por nacionalistas para nacionalistas es que ahora también da la imagen de un corralito familiar

igual que en otro estamentos de este gobierno ahora ya también en la televisión ya es creo

e i te be que si ya está cuestionada su objetividad y en este momento lo está todavía más y los vascos no nos merecemos una etb
totalmente cuestionada por su objetividad nos merecemos una etb veraz y un servicio público eficiente eskerrik asko llanos andrea bukatu da zure denbora eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos la señora bolinaga es empleada de los servicios informativos de e i te be desde el año

tres décadas en treinta y tres años de trayectoria profesional contrastados

ha desempeñado otras responsabilidades no desdeñables ha sido coordinadora de corresponsalía ha sido jefe de política ha sido editora de informativos de noche

ha sido también directora y presentadora de otro programa de debate en etb y ahora ha sido nombrada

no cuestionada que usted tampoco cuestiona su valía profesional lo dice por escrito en su interpelación y lo ha reiterado hoy no la pone en cuestión ahora ha sido nombrada

en televisión a usted afirma e insisto y lo dice expresamente que no pone en cuestión la valía profesional

me está diciendo que a pesar de que no pone en cuestión su valía profesional a pesar de que se trata de una mujer con una trayectoria y un empaque profesional

su esposo es el consejero de cultura en este momento y me dice que si hubiese sido al revés no hubiese planteado esa cuestión y me lo dice una mujer en serio

que queda invalidada con esa trayectoria profesional por esto una

con la aportación que desde ella puede hacer al buen funcionamiento de e i te be solamente porque su esposo en este momento es el consejero de cultura insisto y me lo dice una mujer francamente

eskerrik asko egun on un total de trescientos doce contenedores marcados con el sello de explosivos

meses desde el puerto de bilbao con destino a arabia saudí un cargamento que teniendo en cuenta que cada contenedor tiene una capacidad de alrededor de veintiocho toneladas puede sumar

toneladas medios como la cadena ser o informes de greenpeace o amnistía internacional señalan que lo que transportaba ese barco era armamento armamento destinado

donde está cometiendo entre otras cosas crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos país para el que el parlamento europeo ha perdido un bloqueo comercial de armamento mediante la aplicación del tratado de comercio

por ello señor lehendakari le pregunto qué opinión le merece al gobierno

sea la puerta de salida de armas para países que están cometiendo
crímenes de guerra y otras graves vulneraciones de derechos humanos como es el caso de arabia saudí eskerrik asko eskerrik asko

ezartzen ditu hainbat eta hainbat gai una vez otorgada la licencia por la administración general del estado considerando todas esas actuaciones que usted dice de acuerdo con el comercio internacional el referido

atendiendo a sus condiciones de peligrosidad seguridad y demás en el supuesto de que quien vaya a hacer comercio internacional utilice el medio marítimo sea el puerto de bilbao o cualquier otro este no puede en ningún caso ni oponerse legalmente ni limitar o negar dicho embarque porque se trata de un servicio público legalmente avalado por esa autorización y en consecuencia en muchos casos la autoridad portuaria únicamente tiene que atenerse a las condiciones de seguridad y no puede en ningún caso oponerse a que se realice siempre y cuando la autorización sea legal

no solo le estoy hablando de legalidad es lo que quería decir y de hacer cumplir un tratado y hacer cumplir la legalidad le estoy hablando de ética y de humanismo refiriéndome al lehendakari

que también que son valores compartidos por su gobierno el de la ética

de acuerdo porque es ético seguir vendiendo armas a un país como arabia saudí

dictadura es ético que miremos hacia otro lado

hacia guerras injustas en las que mueren seres humanos inocentes

predominante es coherente nik ez dut uste es cierto señora tapia que no tenemos esas competencias ni en puertos ni en lo que usted decía la de puertos contarán

a nuestra comunidad autónoma pero cuando lo tengamos para que la vamos a tener para cumplir con el tratado de comercio de armas o seguiremos siendo

la pregunta queremos la competencia pero para qué la queremos lo digo

por este tema ha habido movilizaciones este verano tenemos un gran ejemplo en el objeto de conciencia del bombero pero me ha parecido oír

me lo refrenda ninguna petición del gobierno vasco hacia el gobierno de españa para un mayor control de lo que está exportando desde nuestros puertos

estatal curiosamente tampoco hemos oído demasiado sobre ese tratado secreto que firmaron el gobierno español y el gobierno de arabia saudí

no hay competencias señora tapia pero la voluntad política expresada muchas veces en declaraciones incluso en prensa no hace falta ni siquiera una declaración institucional tienen mucho valor un valor simbólico importante en momentos como este y en lugares en los que no tenemos competencias como este y además yo creo que sería un y seguro hasta

mejor en la política desarrollo humano que está inserta en el programa de gobierno y en la estrategia

que tenemos críticas por la parte de la competitividad por eso también aprovecho

iniciativa para anunciarles que exija un mayor control del comercio internacional de armas y que exija también una declaración simbólica y una ruptura simbólica de relaciones políticas y relaciones comerciales del gobierno vasco con arabia saudí eskerrik asko

señor martínez como usted bien decía en valores podemos estar muy de acuerdo pero se trata en este caso de analizar lo que ocurre

de comercio evidentemente hay que analizarlos desde muchos puntos de vista estoy de acuerdo con usted pero una vez que esos tratados de comercio son legales poco se puede hacer sí hay que trabajar para que en esos tratados de comercio estén todos esos valores esté toda esa ética es ahí donde tenemos que trabajar y por nuestra parte señalarle que

aparecen una serie de valores éticos y muy concretos en el desarrollo de la internacionalización empresarial no le quepa ninguna duda que lo estamos considerando y lo vamos a tener en el futuro y por supuesto comparto con usted una cosa muy importante y es que

trabajando para que la transferencia de los puertos de bilbao y de pasaia estén en manos de este gobierno vasco lo vamos a tener que seguir trabajando para establecer una serie de actuaciones

la seguridad del material que se está llevando a otros países sino analizar muy bien en qué condiciones se está llevando para quién y cómo no es menos cierto que en muchas ocasiones también hemos tratado o con tratados hemos trabajado con tratados de comercio que existían con terceros países donde nuestras empresas se han visto perjudicadas y lo sabe usted

empresas de máquina herramienta de este país han sido consideradas como que estaban exportando materiales militares y ahí también tenemos que trabajar

sino en el caso contrario en el que materiales que realmente son importantes para esos terceros países

y esos tratados estén perfectamente organizados creo que es ahí donde tenemos que incidir y no solamente en el último eslabón de la cadena que es por dónde salen y en qué condiciones eskerrik asko

mila esker tejeria andrea egun on guztioi señor lehendakari hoy se presenta el concurso de acreedores de la naval

puede y debe tener una actitud activa en este concurso y aun más creemos que el gobierno debe tomar una participación en esta empresa durante las últimas semanas incluso meses su gobierno ha

declaraciones erráticas dubitativas e incluso contradictorias

por eso yo hoy le pregunto qué estrategia va a seguir este gobierno a partir de hoy y que actuaciones va a desarrollar para asegurar el futuro

berri horren bila beste norbait hartzekodunen konkurtso honetan agertu dadila es por tanto el trabajo que hacemos siempre y que vamos a continuar haciendo hoy a partir de hoy que es el peor de los escenarios buscar la mejor solución para el astillero la que mantenga la máxima actividad y la que mantenga el máximo empleo

la más ordenada posible y a partir de ahora colaborar en buscar esa solución porque no somos un actor activo directamente implicado trabajamos de acuerdo con los accionistas con quién vaya a venir con el administrador concursal con el juez y con los trabajadoras

y quiero dejarlo muy clarito muy clarito lo dijo el lehendakari y lo he dicho yo solamente podemos tomar esa participación y estamos dispuesto a hacerlo una vez que finalice el concurso una vez que la empresa salga del concurso porque solamente con el hipotético anuncio

existe una carta enviada por la dirección general de competencia de europa

cuidado es una empresa en crisis y ustedes no pueden participar ahora ahora no

siempre de la mano de los accionistas del nuevo inversor y de los trabajadores eskerrik asko

que no haya contestado a esta pregunta el lehendakari deja muy claro

de su decisión el concurso de acreedores va a tener su curso y va a tener su propia dinámica

pero la naval el futuro de la naval necesita de cuatro premisas de cuatro condiciones la primera que se reduzca su deuda y para eso se establece el concurso de acreedores la segunda que tenga nueva financiación la tercera que existan nuevos inversores o propietarios y la cuarta que se mantenga la carga de trabajo

el gobierno sí puede y debe tener un papel activo usted dice que no nosotros consideramos que sí tiene que tener un papel activo y tiene que ponerse a disposición

pero yo diría más el gobierno debería liderar ahora me queda la duda de si lo hará todas las actividades que sean destinadas a asegurar a los posibles inversores que en este país

y para eso es preciso constituir una mesa de trabajo una mesa estable en la que estén todas las partes implicadas la representación de los trabajadores y trabajadoras las instituciones todas las instituciones no solamente el gobierno vasco sino todas aquellas que se quieran implicar mostrar al mundo mostrar a los inversores que aquí remamos todos y todas en la misma dirección y no parece que sea así no parece que haya sido así hasta ahora usted dice el gobierno no puede tomar una participación activa en la naval no es cierto el gobierno puede presentar una propuesta de compra vinculante

porque de lo contrario el concurso pasará de la fase común a la fase de liquidación y entonces es cuando posiblemente la naval tenga mucho menos futuro que ahora

desde el dos mil catorce el gobierno sabe cuáles son las dificultades de la naval las conocen perfectamente y hasta ahora han jugado a esconderse pero ese tiempo

ahora mismo ya no es tiempo de esconderse ya no es tiempo de callar es tiempo de comprometerse por eso les pido desde aquí que se comprometan y que lo hagan en firme

sí es legal y si no lo saben pidan los informes jurídicos que correspondan lo que sí le digo es que lo intenten

si no intentan salvar a la naval ni lo

la margen izquierda no se merece menos y la realidad es que a día de hoy ustedes lo único que están mostrando son dudas que aún
llevan más a la naval a su precipicio muchas gracias eskerrik asko becerra jauna tapia anderea zurea da hitza

el compromiso del lehendakari creo que respondió en este mismo lugar en el debate de política general si a usted le parece poco importante me sorprende

hizo alusión a la naval y contestó clara y nítidamente dos papel activo papel activo no ahora es que el gobierno lleva trabajando no ahora sino mucho tiempo

cree usted que han caído del cielo pues el gobierno ha trabajado para que aparezcan para que existan para que se pueda organizar cómo que no existen

bueno usted quizá no es conocedor de que han visitado la naval

bueno el gobierno trabaja activamente para uno

colaborar a que se ordene el concurso porque la naval sigue siendo de sus accionistas y colaborar para buscar inversores ese es nuestro papel activo lo ha sido y lo va a seguir siendo no tenga usted ninguna duda escondernos nunca y seguimos trabajando con accionistas con nuevos inversores y trabajadores hoy mismo sin ir más lejos la última reunión con los trabajadores

buenos días presidenta lehendakari señores y señoras consejeros consejeras señorías señora consejera

y presidenta del consejo rector del ess bilbao otra vez volvemos a hablar de ess bilbao uno de los proyectos científicos enmarcados en otro de los proyectos científicos más importantes de europa pero con una sensación agridulce señora consejera

la situación del programa ess bilbao por un lado la firma del acuerdo del gobierno vasco y el gobierno de españa en relación con las condiciones de entrada de la infraestructura vasca

el momento dulce ahora vienen dos momentos agrios señora consejera por un lado la rebaja de veinte millónes de euros en la aportación que se esperaba del gobierno vasco

de esa inversión por parte del gobierno vasco y un tercer momento también seguramente agrio la dimisión irrevocable anunciada

es decir bueno una buena noticia la apuesta del gobierno de españa por el ess bilbao hace

en la consolidación de ese proyecto pero la otra es esa rebaja esa posición del gobierno vasco in peius en relación con un proyecto aparentemente tan importante como el

en un ejercicio nosotros sí que de realismo qué razones ha llevado al gobierno vasco a rebajar casi el cincuenta por ciento su aportación al programa tecnológico y de innovación que constituye

yo creo que sí porque estamos hablando de lo que estábamos hablando iban a ser ochenta y dos millónes ahora por

o esa rebaja del gobierno vasco van a ser sesenta y dos millónes es decir cómo liga esa rebaja de veinte millónes de euros

de esos proyectos de colaboración con la universidad con las infraestructuras tecnológicas de euskadi con esa colaboración futura con la industria local con la industria científica eso de lo que siempre hemos hablado o sea rebajando esa inversión

claro que hay capacidad a nosotros nos han dicho que hay perfectamente capacidad para que ess bilbao desarrolle la función que tenía que estar desarrollando ya

es que esta situación esta rebaja en la inversión es que no casa no liga con el discurso de política general que atendimos el otro día

esto va directamente en contra o rebaja o disminuye es deficitario en relación con el plan laui es decir si algo es inversión innovación internacionalización e industria el plan laui del lehendakari son exactamente el ess bilbao porque son inversión innovación

el entramado tecnológico del país vasco eso es pues bajar reducir esa inversión veinte millónes de euros precisamente va

de nuestra actividad científica en este país vasco y el del desarrollo

va exactamente en contra de todo eso señora uriarte recientemente el comité de empresa

de ess bilbao hacía una serie de preguntas no sé si se las habrá contestado pero

estamos absolutamente decepcionados con esa actitud reduccionista del gobierno vasco en relación con esa infraestructura

reiteradamente cuáles han sido las razones del porqué

lo que esperábamos en el ámbito de la ciencia de neutrónica como he dicho mantenemos nuestro compromiso íntegro con europa tanto en lo que respecta a la construcción de la fuente europea de espalación como el fortalecimiento y generación del conocimiento de euskadi y como ya les he adelantado el balance de generación de conocimiento y capacidad científica tecnológica e industrial

es muy escaso entenderán que este escenario no es adecuado ya que en estos momentos nuestra capacidad de uso de la infraestructura europea está muy por debajo de lo que será

y las razones son muy claras nosotros pretendemos potenciar nuestro sistema

señores consejeros señorías buenos días a todos hace año y medio el

publicaba el texto que esta cámara había aprobado la ley de instituciones locales de euskadi posiblemente la ley más importante que se aprobó en la pasada

de las más importantes y políticamente con un gran significado era la más deseada eso seguro que sí porque habían sido muchos los intentos de sacarla adelante y las mayorías del parlamento no habían dado el sí lo suficiente hasta que por fin en el dos mil dieciséis

esa ley municipal entró en vigor al día siguiente el quince

del ejercicio pasado esos días el señor erkoreka usted andaba muy contento yo le di la enhorabuena porque sé que efectivamente usted apostó muy fuerte por esa ley y se dejó la piel en las negociaciones previas

y posteriormente en la tramitación en la cámara hasta que al final la ley salió adelante es un hito importante y es muy importante

los ayuntamientos de la comunidad la puesta en marcha de la ley lógicamente lo primero que tiene que aclarar y así lo recoge la ley es la financiación de los ayuntamientos

en la comunidad autónoma para aclarar cómo hay que financiar todas las competencias que tienen los ayuntamientos

tenía previsto que a través del consejo vasco de finanzas se elaborara un informe un estudio un documento sobre los distintos niveles competenciales de las diferentes instituciones vascas

y cuánto cuesta cuánto se está gastando en cada una de esas competencias con las conclusiones de ese informe que se presentará en el consejo vasco de finanzas a esta cámara un proyecto de ley que modifique la actual ley de aportaciones es algo que exige la ley

las juntas generales de los tres territorios históricos y así en todas ellas desde ese momento se han venido aprobando distintas declaraciones o mociones en las que se recoge

de finanzas la ley en sus disposiciones transitorias daba el plazo de un año para que se preparara ese equipo de trabajo y se realizara el informe ese plazo finalizó en abril del año pasado y el informe no estaba hecho en el plazo

se retrasó hasta cuándo no lo sabemos

el diputado general de álava nos dijo que para mediados de este mes de octubre para el catorce o el quince cuando se reúna el consejo vasco de finanzas ese estudio estaba hecho

se traería antes de la finalización del año para la aprobación por parte de esta cámara y que entraría en vigor en dos mil dieciocho estamos en un momento en el que supongo

se reúne el consejo vasco de finanzas y que ustedes digo ustedes porque

y se va a aprobar ese borrador que tendrá que luego venir a la cámara para que se modifique la ley de aportaciones pendiente de esa modificación de la ley de aportaciones están las normas forales de financiación

no se han podido modificar porque ese informe no estaba hecho y la ley de aportaciones no estaba hecha y vamos con un poco de retraso porque en estos momentos

al doscientos por ciento elaborando el proyecto de presupuestos en las mismas

y están todos los ayuntamientos es decir qué vamos a hacer el año que viene cuánto dinero vamos a tener y en qué lo vamos a gastar porque lo tienen que aprobar para que el uno de enero puedan contar con ese documento que es fundamental para la vida de todas las instituciones pero

la semana que viene ustedes van a decidir cuál es o cuál creen que va a ser la recaudación y de qué manera se va a repartir entre el gobierno

cuánto de esa previsión de ingresos va haber para para que ellos pueden hacer sus presupuestos usted sabe señor erkoreka porque conoce muy bien la vida municipal

las diputaciones llaman a los representantes de los ayuntamientos la ley les obliga a hacerlo y les cuentan qué es lo que se ha decidido y de cuánto dinero van a disponer y al día siguiente o a los dos días de esa reunión cada ayuntamiento cada secretario municipal está llamando a las diputaciones para que me des la cifra

porque nuestros ayuntamiento viven fundamentalmente del dinero que

yo lo que hoy le pregunto señor erkoreka es por qué ese informe llega ahora en octubre espero que me diga que efectivamente que la semana que viene presentarán el informe y el borrador de la ley de aportaciones que llegará aquí

me sorprendería mucho que me dijera lo contrario pero se han saltado la ley

y no lo hicieron por qué motivo no lo hicieron por qué van a producir ese quebranto a todos los ayuntamientos que no saben

pero es que ya no contamos con las normas antiguas ahora tenemos

y la distribución que haga cada una de las diputaciones también va a ser diferente ya de entrada

y no ha dado tiempo para que se tramiten esas normas entraran en vigor en el diecinueve cuál ha sido la causa

no encuentro por qué entiendo que no es fácil porque aquí estamos hablando de que si varían los porcentajes lo que se le dé a uno

lo que hasta ahora ha venido manejando es una situación delicada pero la cámara ha pedido que se haga y las cámaras

por qué se ha retrasado a qué viene ese retraso de esos seis meses para que esa nueva normativa no entre en vigor hasta el año que viene esa es mi pregunta cuál es el propósito de ese incumplimiento de la ley muchas gracias

sailburuok legebiltzarkideok señor ruiz de arbulo le quiero

que después de escucharla pues tenga otra impresión sobre lo que usted llama incumplimiento de la ley

está bien pero me gustaría que le preocupará todo los incumplimientos de todas las leyes bien comparto

usted sabe que el propio dieciséis de diciembre al poco de tomar posesión como consejero

tuve que reconocer que era necesario más tiempo para elaborar la nueva ley de aportaciones y que así se lo había trasladado a los tres diputados generales

ekarpenen lege berri bat diseinatu eta onartzeko beharra dagoela afirmé además como recordará que el gobierno necesitaba abordar diversas cuestiones que condicionan el desarrollo de la misma

la primera y muy relevante tal y como usted indica en su planteamiento es el mandato establecido en la ley

un informe sobre las competencias de los tres niveles institucionales y su financiación

se deberán trasladar al resto de los extremos a los que se refiere la ley de la instituciones locales de euskadi a la nueva ley como también decía usted de aportaciones los ayuntamientos que ahora sí están representados en el consejo vasco de finanzas

nueva ley así en febrero de este año se conformó un grupo de trabajo que se encuentra desarrollando dicho informe no es fácil como usted también ha señalado el grupo constituido con representantes de todas y cada una de las instituciones que

se ha dotado de una metodología de trabajo ha elaborado a título de borrador un de los eventuales contenidos del informe

toda la documentación necesaria para configurar el grueso del mismo que como usted bien indica de gran importancia y créame señor ruiz de arbulo si le digo que tampoco resulta sencillo la aproximación a un debate que concierne a los tres niveles institucionales

entre la cobertura financiera de las diversas políticas públicas definiendo entre todos las prioridades de las mismas y las legítimas aspiraciones de cada administración de contar con la mejor financiación para sufragar los servicios que cada una de ellas presta

oreka konplexua landu behar dela bertan afirmé además que el gobierno vasco considera que es vital diseñar una ley de fondo

y que genere suficiencia financiera para abordar las prioridades de los próximos años se debe buscar un modelo de estabilidad y que tenga en cuenta las características

le aseguro que es un trabajo que se está llevando a cabo de forma minuciosa y por ello efectivamente va con el retraso

era una fecha que estaba ahí pero entendemos que es más importante hacerlo bien

por eso le digo que prefiero pecar de cauteloso y conseguir diseñar la mejor ley de aportaciones para euskadi y fíjese que ha coincido en el tiempo que las instituciones vascas han sido capaces

diez años de desencuentros financieros con el gobierno del estado por lo que tenemos un horizonte mucho más previsible a la hora de poder realizar las estimaciones económicas me refiero a la firma de los acuerdos en la comisión mixta de concierto económico

ley de concierto económico que aportan una paz fiscal a euskadi que permite continuar desarrollando el informe

de manera mucho más fiel a la realidad con más servidumbre y con más seguridad como usted sabe estas leyes tienen que pasar por el congreso y el senado para ser aprobadas lo cual sucederá este mismo año tal y como se firmó con el gobierno de

por lo tanto vuelvo a anteponer señor ruiz de arbulo la confección sólido riguroso y consensuado entre todas las instituciones implicadas que coadyuve a la elaboración de una buena ley de aportaciones que es lo importante

con todo el respeto que me merece el mandato de este parlamento en lo que ha dicho plazo se refiere

el señor erkoreka ya me habían indicado que posiblemente me iba a responder usted no es que yo

en su respuesta llego el dieciséis de diciembre al gobierno

sí estaba en el gobierno anterior si estaba cuando se aprobó la ley que no es un mandato baladí

legal que hay que cumplir y no podemos dejar de cumplir una ley para decir no es que vamos a hacer un trabajo muy bueno claro

porque en febrero fue cuando se empezaron las reuniones del grupo de trabajo

hasta febrero de dos mil diecisiete no se ponen a trabajar porque puedo entender que se podría

y que hasta que el nuevo gobierno no llegue y tome posesión no se va a poner en marcha

no es real porque es un equipo de trabajo absolutamente técnico y el mandado de la ley no dice en el plazo de un año salvo que haya elecciones no dice que en el plazo de un año se haga y los técnicos podrían haber estado trabajando

pero no se les convocó y no se empezó a trabajar usted me dice que se va a retrasar yo pensaba que iban a presentar ese informe la semana que viene

las normas forales correspondientes de distribución de esos fondos entre los distintos niveles competenciales municipales

por qué no se ha hecho una causa tiene que haber porque cuando se elaboró la ley

muy complejo que era una cuestión muy delicada pero se puso un plazo y lo aprobó la cámara pero es el plazo que propuso el gobierno que era el que se tenía que encargar de promover esos trabajos

ustedes están incumpliendo voluntariamente la ley con la escusa de que quieren hacer un trabajo muy bueno muy fino y muy consensuado

llegó aquí en diciembre y ha hecho todo lo posible pero no ha dado tiempo por eso yo le preguntaba al señor erkoreka quien sí estaba en el consejo vasco de finanzas

esos trabajos en aquel momento el gobierno anterior lo tenía que haber hecho pero claro no es una responsabilidad solamente de este gobierno y ante esta cámara

ante las tres juntas generales de los tres territorios históricos por qué le han engañado al diputado general de álava que sale diciendo que para el dieciocho está hecho

ya ya ya alguien le ha dicho que va a ser así o él pretende engañar a todos los demás no lo sé si está dentro señor erkoreka usted me contará me encanta que no me responda a la tribuna pero lo haga desde el escaño de verdad

cambiando el debate continuamente alguien le ha engañado o él ha pretendido engañar a todo el mundo las juntas generales de bizkaia también lo han pedido y los de gipuzkoa también lo han pedido pero no se hace

por qué se ha retrasado durante todo ese tiempo por qué

hasta febrero del diecisiete no se empezó a trabajar sabiendo

que tenían el fondo de la cuestión y la complejidad que tenía ese informe y lo difícil que iba a ser consensuarlo esa es la
respuesta que espero o bien desde el escaño o bien desde la tribuna me den los miembros del gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

arbulo aunque no creo está usted muy abierto a entender hoy lo que le estamos diciendo dice que hay que

y antes le he dicho yo que estábamos demorando el complimiento de este compromiso para hacer una buena ley

de otras leyes para hacer unas buenas transferencias por ejemplo pero bueno al margen de esta cuestión

hasta el momento actual con la ley de aportaciones la ley de aportaciones actual del año diecisiete perdón del año dos mil siete hasta el dos mil once es decir llevamos seis años en prórroga

perfectamente porque está previsto el mecanismo de prórroga la nueva ley pretenderá o tratará o

no hay ningún problema y araba tampoco tiene ningún problema para tener los recursos suficientes para financiar sus políticas

la ley funciona la actual habrá que hacer otra sí lo haremos cuándo cuanto antes cómo una buena ley y espero que así sea además

del retraso pero tengo que decirle que prefiero tener una buena ley

que no una mala ley no es fácil

pues el tema electoral claro que ha sido importante ha habido muchos factores sabe usted que este análisis se hace para analizar la distribución

como sabe todas las instituciones quieren defender el máximo la cuestión es que suma cien

si alguien tiene más que antes el otro tendrá menos con lo cual eso tendrá que estar muy sopesado

nadie está dispuesto a cambiar la situación pero no hay ningún quebrante institucional ni mucho menos

y que lo hará bien aunque sea un poco más tarde el objetivo primordial insisto es la elaboración y aprobación consensuada de una nueva ley de aportaciones una ley de fondo

suficiencia financiera para abordar las prioridades de los próximos años suficiencia financiera para los tres institucionales los entes locales por supuesto también

compartimos ese mismo objetivo señor arbulo no le quepa la menor duda ser capaces de elaborar una ley

cómodos y nos permita ser fieles a los compromisos adquiridos por la ciudadanía una ley de aportaciones que asegure nuestro presente y abra

muchas gracias señora presidenta señora consejera nosotros el cinco de septiembre pedimos su comparecencia con urgencia para explicar

las crisis de determinadas empresas que durante todo el verano y después del verano han seguido apareciendo en los medios de comunicación

es que como la señora consejera sabe se ha pasado ya más de un mes en la prensa

y por lo visto la señora consejera no piensa comparecer en este parlamento hasta mediados del mes que viene para explicar la actuación del gobierno

y por lo tanto nosotros lo que queremos saber es por qué la señora consejera tiene tantas reticencias en comparecer en este

para solucionar los problemas de estas empresas eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señor damborenea tengo que compartir con usted y con esta cámara

realización de esta pregunta por qué es sorpresa porque desde luego conocía de la existencia de la hipotética existencia de esta solicitud por la prensa

en contacto por parte de la comisión con ningún miembro de mi departamento evidentemente tampoco conmigo para proceder a realizar la comparecencia hasta el pasado día dos de octubre lunes el mismo día que usted registra esta pregunta sabe perfectamente que

es más una vez que se ha puesto en contacto la presidencia de la comisión para realizar esta comparecencia hemos establecido el día pero no solo eso no he comparecido porque no se me ha llamado porque sabe también que he comparecido desde el pasado mes de septiembre en tres ocasiones en esta comisión de desarrollo económico e infraestructuras para explicar la ley de sostenibilidad energética

para explicar la ley de emprendimiento y el próximo día dieciséis tenemos fijada fecha

y espero que tengamos también ocasión de hablar de estos temas aunque en el futuro también hablemos concretamente de las empresas

algunas en concurso y otras no ningún inconveniente en venir todo lo contrario y lo demuestra que en el plazo de mes y medio habré venido cuatro veces eskerrik asko

precisamente por eso porque la señora consejera ha comparecido en estos últimos quince días tres veces en este parlamento para hablar de otros temas es por lo que nosotros discrepamos con el presidente de la comisión cuando nos dijo que era un problema

por qué porque lo mismos que ha comparecido para unas cosas podría haber comparecido para las otras y cuando

yo me lo creo casi todo señora consejera y le creo a usted al noventa y nueve coma noventa y nueve

que según entra una iniciativa en el registro del parlamento el gobierno la recibe

sin pasar por la mesa por lo tanto usted sabe y su departamento sabe y ustedes conocen desde el día

porque a mí me consta que ustedes lo reciben y usted sabe que nosotros habíamos pedido esa comparecencia pero le tengo que decir algo más a mí

no no sí sí o sea no solo ha comparecido usted ya tres veces va a comparecer más veces

no va a venir a comparecer para hablar de las empresas en crisis en este parlamento que es lo que se nos ha dicho el otro día en la comisión pero a mí lo que más me sorprende no es que nosotros lo hayamos pedido y parece que sea una comparecencia molesta para la consejera es que lo que no entendemos es que la propia consejera de motu propio

ni la consejera ni el gobierno o sea la primera explicación en todos estos meses del gobierno sobre esta materia la hemos tenido a la respuesta de una pregunta anterior

en varios meses que el gobierno viene al parlamento a hablar de este tema y lo que nos extraña es que la propia consejera a petición propia

lo suficientemente urgente que treinta y seis empresas como dijo el lehendakari

no sea un tema en el que haya que dar ninguna explicación o explicar que se está haciendo en este parlamento

lo dije el otro día ayer mismo aquí en la tribuna estoy seguro de que la

para encontrar inversores para todas las empresas y espero que tenga mucha suerte pero lo que no puede ser es que el gobierno

y que se está haciendo para solucionar esos problemas y ya sé que ha comparecido tres veces y va a comparecer más
pero le seguimos pidiendo que comparezca para hablar de estos temas eskerrik asko damborenea jauna tapia andrea zurea da hitza

dar lecciones a nadie ni analizar cómo se tiene que hacer ese trabajo esta comparecencia es igual de molesta o poco molesta que son las demás yo no tengo ningún problema y usted lo sabe en comparecer para contar todo lo que se está haciendo por parte del gobierno pero es que parece que

cuando llevamos toda la legislatura pasada no con cuatro empresas en crisis si no con una situación impresionante de la que por suerte

se está saliendo por tanto ningún inconveniente y trabajaremos y lo contaremos y hablaremos tal como lo hemos hecho no ahora no en estos dos meses y en estos tres en todo el tiempo que llevo yo en esta legislatura y me consta que los que me han precedido en el cargo han hecho cosas similares por tanto especificaremos todo lo que se está haciendo y el día que se presente el plan de industria también hay un apartado en ese plan de industria como usted sabe pymes empresas en dificultades en las que también tendré ocasión de explicar cuál es el procedimiento y como se trabaja con las empresas en dificultades porque las dificultades pueden ser de muchos tipos

y otras dificultades de otro tipo que no llegan a ser públicas y que desde luego hay que tratarlas con mucho cuidado como usted sabe los procedimientos concursales tienen un procedimiento tasado pero existen muchas otras situaciones que hay que tratarlas de una forma mucho más concreta y tendremos ocasión de verlos el día dieciséis no obstante

en hablar de todo lo que sea necesario con la comisión y con los señores y señoras parlamentarios eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

porque el número de perceptores de prestaciones se reduce mucho más que el de desempleados lo que provoca un aumento insoportable de las personas sin empleo y sin protección

en favor de las asistenciales con una reducción significativa de la cuantía del gasto por persona beneficiaria porque se reduce también

esta situación afecta además especialmente a las mujeres que además de menos protegidas

prestaciones todo ello está provocando una caída acelerada en el gasto por desempleo en los últimos meses que demuestra la dureza del recorte del sistema de protección de la reforma del dos mil doce y eso nos afecta notablemente gainera bilakaera oso oso kezkagarria da espainiako gobernuak prestazioen egindako murrizketen ondorioz

y como bien usted lo ha matizado en lo que ha sido su intervención este sistema de prestaciones por desempleo es competencia del estado por ello

estima inadecuada para aquellas personas de difícil situación o en difícil situación y que nosotros en parte compartimos corresponde a otra administración lo que es su gestión la gestión de las prestaciones por desempleo no es una competencia transferida a esta comunidad autónoma las condiciones los criterios de acceso los marca el estado y eso

el desempleo es el máximo exponente de la crisis económica que hemos padecido y es el principio de otros tantos problemas para las personas afectadas y el sistema estatal de protección por desempleo tiene como eje central la prestación contributiva con la que pretende compensar la pérdida del salario en las situaciones de paro así se proporciona una ayuda del setenta por ciento de la base

y el cincuenta por ciento desde el séptimo mes cuando se ha cotizado al menos trescientos sesenta días

esto limita el acceso a la protección contributiva a los colectivos con empleos de corta duración y también la elevada rotación laboral la escasa duración de los contratos

y a la juventud como usted también destacaba en cuanto a los subsidios están destinados a aquellos desempleados que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo

en cualquier caso su alcance es temporal y por todo ello que el sistema estatal de protección es un sistema limitado e insuficiente que incrementa la vulnerabilidad y en último término la exclusión social que golpea a los sectores

ante esta realidad desde el gobierno vasco consideramos imprescindible contar como herramientas públicas como nuestra renta de garantía de ingresos que compense ese déficit y en euskadi así lo dice los datos la renta de garantía de ingresos ha conseguido paliar

y por la mala cobertura de las personas desempleadas las prestaciones de nuestro sistema de garantía de ingresos directamente

de exclusión lo que supone que un noventa y seis coma seis por ciento de las personas de este colectivo

prestaciones complementarias de vivienda por tanto consideramos que el sistema de protección vasco es el principal colchón social de las familias hoy en riesgo de pobreza de euskadi

si analizamos los datos del pasado mes de septiembre el número de personas desempleadas en las oficinas de lanbide ha disminuido en mil ciento sesenta y cuatro personas y como bien decía usted todavía tenemos ciento treinta y dos mil personas en desempleo

tiene una lectura positiva ya que nos acercamos a patrones evolutivos ajustados a los comportamientos del paro en los años anteriores a la crisis el saldo interanual

y después de unos meses en los que se había detectado una leve deceleración en el ritmo de descenso interanual del desempleo

es buena son datos positivos y nos estimulan a seguir en este camino pero no podemos olvidar todavía que hay personas en euskadi que viven situaciones complejas a las que debemos atender para que nadie quede atrás y somos conscientes de nuestro compromiso con quien peor lo está pasando

del total de las personas desempleadas en septiembre el veintiocho coma nueve por ciento de ellas está percibiendo alguna prestación por desempleo o subsidio

pero esto no significa que en euskadi estas personas estén desamparadas o desprotegidas coincidirá usted conmigo que el sistema vasco de protección interviene positivamente en aquellas situaciones que cumplen los requisitos para que estas personas tengan una ayuda según los datos de lanbide

y dentro de este colectivo tenemos que tener en cuenta que es un colectivo

el sistema vasco de protección está basado en el doble derecho y por un lado la ayuda económica y por el otro lado la inclusión laboral mediante políticas activas de empleo este gobierno desarrolla programas de políticas activas de empleo y de prestaciones de garantía de ingresos

el gobierno vasco junto con otras instituciones forales y locales han venido invirtiendo desde el año dos mil doce hasta el dos mil quince dos mil trescientos millónes de euros en políticas sociales para la inclusión

comparativamente en euskadi hemos invertido más que en las comunidades de nuestro entorno en prestaciones de garantías de ingresos les he trasladado en numerosas ocasiones

y el esfuerzo que esta sociedad hace para que las personas no caigan en la exclusión social

esta red permite que las personas residentes en euskadi puedan mantenerse tanto en cuanto las políticas activas no les permitan acceder a un puesto de trabajo somos conscientes

y es por ello que las políticas activas de empleo son la herramienta fundamental para incrementar

para ello nuestro plan de acción en este terreno abarca nueve ámbitos las pymes economía social y el desarrollo económico

el fomento del emprendimiento la promoción del empleo juvenil la formación para el empleo incentivos en la inserción laboral el programa renove de rehabilitación el empleo público la mejora de la calidad del empleo y la mejora del sistema vasco de empleo

y especialmente nuestro compromiso se centra en disminuir el desempleo juvenil

incrementar las posibilidades de acceso al empleo a las mujeres y reducir el desempleo de larga duración así también los colectivos de personas discapacitadas son varios los programas e iniciativas destinadas a la situación laboral

basado en las personas y en las empresas y también que sea moderno y eficiente el porcentaje de personas que acceden a un contrato laboral tras haber recibido algún servicio por parte de lanbide

y diversos estudios nos dicen que el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social inserta en el mercado

hace que sea más activables y también reinsertables en el mercado de trabajo tal y como recogemos en el documento de bases para la modificación de la ley de garantía de ingresos

para aquello para lo que fue diseñado para paliar las insuficiencias del mercado de trabajo y vivienda y los sistemas de pensiones y desempleo

cubrir las carencias que el estado no ponía o no protegía de la forma más adecuada a estas personas que se encuentran en situación de desempleo

en lo que se refiere al mantenimiento de los ingresos de una parte de la población es evidente que la política de garantía de ingresos ha tenido un éxito sustancial en euskadi en la prevención de los procesos de empobrecimiento

a haber contribuido a situar a la mayor parte de la población vasca lejos de la cronificación de la pobreza yo para concluir esta primera intervención le diría que lo que usted solicita en su pregunta como lamentable nivel de cobertura

que tenemos en esta parte de europa teniendo en cuenta de quién es la competencia en las prestaciones por desempleo

nuestro compromiso y en base a nuestras competencias es seguir trabajando en el doble derecho en la activación laboral y en la protección social cuando esta sea necesaria

o no un día pertenecer a un estado independiente pero a nosotros sí a nosotras a nuestro grupo sí lo tenemos muy claro y sobre todo nos gustaría pertenecer a un estado independiente precisamente por este tipo de cosas para poder gestionar las cosas de otra manera

que son las cosas de comer que otras personas nos dicen que a nosotros

nosotros queremos construir un estado decente un estado que no deje a nadie de lado ni en la cuneta y creo que en eso deberíamos coincidir

integrales tener todas las competencias para ello y desarrollar un sistema de protección cada vez más amplio horretara horretara hasieran esan bezala

yo creo señora kortajarena que en lo fundamental y en lo básico compartimos

a la hora de poner encima de la mesa cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar como país como modelo de país de protección a las personas que se encuentran

con el objetivo de conseguir la mayor autonomía y autogobierno para este país y poco a poco hemos ido consiguiendo transferencias que han venido a beneficiar la situación en la que los ciudadanos y ciudadanas vascas estamos y si quiere bueno tenía

de la gestión económica de la prestación de desempleo tal y como figura en el informe zubia

en él se recoge que en euskadi desempeña desde hace ya más de diecisiete años desde el dos mil diez

y este informe considera que con el traspaso de la gestión del sistema de protección social por desempleo que incluye las prestaciones específicas y los subsidios se mejorará y se mejoraría de forma muy importante

y estatal en la política de empleo y por tanto en la calidad

que se encuentran en desempleo tienen el nivel de cobertura social para quienes están buscando empleo para quienes tienen una situación de desempleo en euskadi

y para mejorar la situación y los resultados así lo evidencian creo que nuestro compromiso es con todas las personas desempleadas

y las personas desempleadas que no reciben cobertura por parte del estado en euskadi están protegidas por el servicio social vasco por tanto

es proteger a esa parte de la sociedad vasca a esa parte de los desempleados vascos que no tienen ninguna cobertura porque desde el estado no se les protege porque

el traspaso de la transferencia para intentar mejorar la protección de la gestión económica de esa transferencia nosotros estamos dando una respuesta vulnerable en euskadi ese setenta y uno coma uno por ciento que no tiene nada no tiene una cobertura por parte del estado se la está proporcionando este país

que está ayudando a mucha gente y que creo que tenemos que seguir

en el congreso de los diputados su grupo parlamentario igual que el nuestro podamos

una apuesta para que realmente se nos transfieran esas competencias que en el estatuto de gernika no están transferidas y que vendrían a mejorar sustancialmente

simplemente recordarle que desde las competencias de las que sí tenemos

y también desde la parte asistencial con las prestaciones sociales estamos atendiendo a estos colectivos por tanto ya hemos solicitado su transferencia esperemos

señores consejeros señorías señor consejero señor arriola usted y su departamento mejor que nadie deben de saber que esta primavera verano

vertidos contaminantes al dominio público hidráulico del país vasco vertidos en algunos casos que se producen con cierta periodicidad

que se vienen produciendo reiteradamente y algunos los conocemos de primera mano en el último año setenta y dos vertidos contaminantes en álava

salvatierra y la depuradora se llevan la palma pero también hay otros puntos en vitoria y trespuestes

pero ha habido vertidos en markina con presencia de peces muertos vertidos en el nervión en amurrio en llodio también con presencia de peces muertos vertidos en la ría del nervión en bizkaia vertidos en pasaia vertidos en amezketa en mutriku entre otros puedo seguir

se aprecian niveles altos de contaminación y lo dice el informe de la confederación hidrográfica del ebro informe de control de sustancias peligrosas

en cuanto al agua y sustancias prioritarios que es una analítica que se hace conforme a la directiva europea y que como dice la directiva

puede tener efectos agudos y o crónicos los resultados son catastróficos

se han detectado catorce incumplimientos de concentración máxima

el río zadorra se lleva la palma sobre todo el trespuentes

también el zadorra se lleva la palma en puntos de vitoria

el zadorra por delante de todos los demás puntos de análisis

prioritaria también sobrepasamos todos los parámetros el cobre también sobrepasamos en trespuentes el cromo en salvatierra pero también en vitoria en trespuentes

igual manera en el zadorra en trespuentes el plomo señor consejero tenemos un problema esto no es nuevo por otra parte porque ya el informe de estado de las masas de agua de la comunidad autónoma del país vasco de finales de dos mil quince ponía de manifiesto

un dieciocho por ciento de los embalses un ochenta por ciento de los lagos y un noventa y tres por ciento de los estuarios no cumplen con los objetivos de la directiva marco la reiteración de vertidos en un mismo punto

varias veces provoca que la red hidrográfica sufre un grave deterioro y como dice la directiva europea se puede convertir en crónica

y suponemos que en algunos puntos es ya crónica por ejemplo como le decía en salvatierra y en el entorno

pero es que en álava el setenta por ciento de los ríos presenta un estado ecológico

esa calificación que se hace peor que bueno por no decir malo en el país vasco la mitad de los ríos no alcanzan los objetivos que fija la directiva marco nuestra situación señor consejero coincidirá en lo que respecta a calidad de igual

ampliamente mejorable y en algunos casos urge mejorarla

alarmante me dirá que los planes hidrológicos ya recogen las medidas y que vamos aplicando según disponibilidad económica para afrontar las inversiones porque son las inversiones yo creo que aquí además de las inversiones necesarias que ya estamos en ello y que insistimos en la necesidad de que se acometan con la mayor celeridad posible

otra cantinela que ahora ponen por delante de todo que es una gestión centralizada que es paralela también nosotros creemos que hay un margen de mejora

amplio porque si nos ceñimos a casos concretos de un vertido y le voy a decir un vertido en salvatierra un viernes a la tarde

un lugar tercermundista lo avisa un paseante no aparece nadie hasta el día siguiente no hay controles no hay protocolos

no hay la verdad es que es impresionante impresionante

cuál es el protocolo que tienen ustedes establecidos para cuando hay un vertido

qué pasa cuando una depuradora se para como es el caso este no hay ninguna alerta aquí nadie no llega una alerta a la diputación no llega una alerta a ura bueno al ayuntamiento de salvatierra no llega nada

de que nada pase por allá desconocen que tienen una competencia de gestión pero es que cuando un ayuntamiento no ejerce su competencia ustedes qué hacen dejamos que siga contaminándose el río alguna actuación tendrán que hacer ustedes

que tenemos algunos puntos muy complicados en la calidad del agua y este es un tema muy serio se está convirtiendo como le decía

hay distintas circunstancias nos decían en markina cuando hubo el vertido

ahí llegaron representantes de ura representantes de la diputación

un pez para analizar cosa que a los pocos días hubo un vertido en la puebla treviño

nosotros qué hacemos quién hace las funciones en el país vasco que en el resto de españa hace el sector pues es que este verano

y creo que tampoco en otras ocasiones pero yo creo que requiere de que avancemos y mejoremos en la gestión de estas circunstancias

una calidad del agua mala en un setenta por ciento de los ríos de álava y en algunos puntos la situación es muy crítica y le decía

ustedes tienen algún sistema de coordinación entre administraciones competentes cada una en un área

y que luego me remitirá usted a esa propuesta que ustedes anuncian en prensa que es de una gestión única pero es que eso

entonces no nos podemos remitirá a inversiones futuras y a gestión futura

por lo tanto qué podemos hacer qué se puede hacer qué proponen ustedes desde su departamento para corregir estas situaciones

las industrias las empresas cuando van a darse de alta van a hacer una actividad

a salvatierra en concreto hecho que es un punto

tenemos una empresa moderna desde hace diez años instalada que probablemente su depuradora que ustedes o su departamento

no sabemos creemos que igual no ha funcionado nunca que vierte todos sus residuos directamente a la depuradora con lo que conlleva eso

complicadas de tratar para eso se le pidió desde el departamento que tenga una depuradora propia y probablemente igual hasta este verano ya por ciertas alarmas creemos que ha podido funcionar entonces

quién la tiene que hacer también la tiene que hacer el ayuntamiento no lo sé yo pregunto y si no lo hace el ayuntamiento qué hacemos y luego

que porque llevan mucho tiempo no tienen un plan de medidas correctoras

a zonas con acuíferos y con ríos y que puede haber vertidos y

hace un año por las industrias entorno a salburua itsasmendikoi lo que es así

no tiene un plan de medidas correctoras por ejemplo empresa pública por ejemplo y otras tantas del entorno y no pasa nada no se hace nada

me gustaría si ustedes están pensando en esto qué podemos hacer al margen de esas dos

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz

antes de entrar a responder a la parte interrogativa de su interpelación sí me gustaría hacer algunas precisiones sobre las consideraciones que

inobjetables durante estos meses se han dado episodios de vertidos contaminantes en algunos ríos de nuestra comunidad unos vertidos incontrolados

en el valle de ayala son como usted bien sabe dos puntos conflictivos en el primer caso por la deficiente gestión

que esperamos se pueda resolver con la nueva depuradora que se ha comprometido a construir ura y en este sentido le anticipo que en próximas fechas vamos a firmar

un convenio para poner en marcha esta infraestructura así como un modelo de gestión que sea más eficiente

por la falta de la red de colectores y del sistema de depuración que como conoce

corresponde ejecutar al gobierno central recientemente en marzo salió información pública el proyecto de los colectores y de la depuradora de basaurbe

a la correspondiente investigación por parte de la agencia vasca del agua y en el caso de que se logre identificar a los responsables se aplicará las sanciones pertinentes

recogido en el informe de ura creo que lo ha elegido precisamente los datos más favorables no tiene sentido negar las carencias que existen y cerrar los ojos a los problemas que siguen subsistiendo en las masas de agua en euskadi cuando precisamente vienen recogidos

por supuesto que hay esos problemas pero no corresponde a la realidad afirmación que hace su interpelación de que la situación está empeorando de forma considerable

iniciados por el gobierno vasco desde los años noventa indican una progresiva y clara mejoría en la calidad del agua

de la misma así se concluye de los distintos informes y trabajos que al respeto elabora la agencia incluyendo los informes anuales de las redes de control los planes hidrológicos entre otros esto sí resulta clara

cuestión que desde el departamento agradecemos de forma resumida se puede resaltar que en dos mil ocho

alcanzaban el buen estado ecológico en la actualidad con datos del dos mil dieciséis este porcentaje es del cincuenta y dos por ciento

pasando de un cumplimiento del ochenta y nueve por ciento en el dos mil ocho al noventa y dos por ciento en la actualidad

creo que era pertinente hacer estas puntualizaciones antes de entrar a responder a la interpelación que me formula está haciendo y va a hacer el gobierno vasco para evitar vertidos contaminantes en el dominio público hidráulico y mejorar la calidad de las masas de agua en euskadi

señalar en primer lugar la realización de vertidos al río o al mar

requiere de la autorización previa que debe tramitarse ante la agencia vasca del agua y en la cual se establecen los límites de vertido y de resto de condiciones que debe cumplir actualmente

de los cuales cuarenta y seis los correspondientes a aglomeraciones de dos mil habitantes o equivalentes más de dos mil habitantes o equivalentes suponen más del noventa por ciento

para controlar que dichos vertidos autorizados cumplen con las condiciones exigidas por la autorización se ha realizado a lo largo de este año concretamente hasta el uno de septiembre

y se han tomado mil ciento setenta y siete muestras de vertido por parte del personal de ura así mismo se han recibido y contrastado

facilitadas por los titulares de las autorizaciones de acuerdo con las condiciones de esas autorizaciones ura tiene identificado que una parte importante de estos vertidos autorizados se producen en actividades ubicadas

o incluidas en el ámbito de una aglomeración por lo cual

residuales dichos vertidos deben ser conducidos a la red de colectores

correspondiente estamos trabajando con las administraciones locales

en la prestación del servicio de saneamiento con los consorcios y mancomunidades

conexiones a colector y minimizar así el número de vertidos en los ríos y a la mar

de la carga contaminante así mismo desde ura se hace una labor en continuo de identificación de vertidos sin autorización

regularización o eliminación para los casos en los que debido

ura cuenta con un servicio de guardia de veinticuatro horas todos los días del año

el ciento doce dependiente de la dirección de atención de emergencias del gobierno vasco trabaja para minimizar los efectos del vertido in situ valorar el impacto que se ha producido en el rio o costa

responsables del mismo en lo que llevamos de año

de ellos se han identificado a responsables en ciento cincuenta y seis casos aunque no siempre es posible tomar muestras a tiempo y precisar dónde ha estado el origen

sancionadores en total en la labor de control de los vertidos que se producen tanto a ríos como al mar

se han tomado mil doscientos cuarenta y siete muestras se han emitido

y se han iniciado veintisiete expedientes sancionadores no obstante

impacto de los vertidos a los ríos y a la mar proviene de los usos urbanos del agua relacionado con el servicio de saneamiento

intensamente en este ámbito una parte importante de las inversiones presentes y futuras de la agencia están dirigidas a completar los sistemas de saneamientos y depuración pendientes en los tres territorios

en agurain esta última muy importante para mejorar el estado del zadorra también en álava ura dispondrá de los suelos por las depuradoras del alto nervión y soluciones claves para que restaure el estado de este rio en bizkaia se está ejecutando las obras de saneamiento del corredor gernika depuradora del arriaran que solucionarán el estado del rio oka que se atraviesa

también se acometerán las obras de los nuevos colectores de ermua en mallabia que solucionarán el estado de cabecera del rio ego afluente

para solucionar los problemas de vertidos en el barrio de mijoa en mutriku

en pasaia y donibane pero también es fundamental

abastecimiento y saneamiento por parte de consorcio y mancomunidades de administraciones locales

técnica y económica para abordar dicha labor lo cual redundará

de la carga contaminante vertida no se trata tanto

de ese mantenimiento que como usted sabe no es

sino que son las administraciones locales y en ese sentido trabajamos y vamos a trabajar para que podamos optimizar esas inversiones y por supuesto con todo esto

de que esa gran labor que se viene realizando en los últimos muchos años y que todavía queda tanto por hacer de conseguir la calidad de aguas

sea adecuadamente también contrastada con una labor de inspección

señor consejero se habrá quedado muy tranquilo con su intervención pero no ha respondido nada a lo que le he planteado o sea como casi siempre por no decir siempre

de unas realidades que son serias y que las consecuencias como dice la directiva marco del agua pueden ser

pero es que usted yo quiero pensar que se lo toman en serio pero no demuestra

me dice que ha mejorado los porcentajes medios de calidad del agua sí en algunos puntos pero en álava lejos de mejorar empeoran y por qué

hacer las inversiones que ya vienen desde el siglo pasado voy a decir que se concretaron en un acuerdo marco del dos mil cuatro

tiene como consecuencia esto porque si eran necesarias la depuradora de agurain en el año dos mil cuatro hoy no le voy a contar lo que es

y claro me dice hemos firmado un convenio con el ayuntamiento de salvatierra yo no tengo contra salvatierra quiero mucho a salvatierra el cincuenta por ciento de

pero soy muy amiga del señor beraza hoy alcalde

se lo digo a él lo digo aquí y lo digo donde haga falta y por lo tanto no sé qué ha firmado usted con el señor alcalde pero es que también firmó un convenio en el dos mil cinco con la diputación de álava es igual

este ayuntamiento y la gestión que se hace ya se ha quedado casi crónica por lo tanto

de agurain pero el diputado de medio ambiente de la diputación de álava habla de otras fechas y el diputado de medio ambiente hace un plan de saneamiento y

entonces ustedes tampoco están muy de acuerdo y muy coordinados

por lo menos por lo que vemos en prensa por lo tanto señor consejero los ayuntamientos tendrán aquel y sus competencias pero usted tiene la obligación de liderar de coordinar actuaciones para prevenir que se produzcan los vertidos porque dónde está en su departamento la parte preventiva estamos hablando

que hacemos después de los vertidos y qué hacemos para prevenir que haya vertidos qué hacen ustedes para prevenir me dice ura tiene un sistema de veinticuatro horas de alerta

ciudadana de la calle voy veo un vertido en un río y sé que tengo que llamar al ciento doce

es que creo que eso tiene que tener un protocolo mucho más formalizado mucho más exigente

nos estamos jugando que algunos puntos se queden como crónicos contaminados en las aguas y en los sedimentos y eso tiene una repercusión

en la flora y fauna de los ríos por lo tanto señor consejero me gustaría

que usted demuestre que está preocupado y que esto le preocupa y que además quiero saber y me gustaría saber qué están dispuestos ustedes a hacer en la gestión diaria al margen como le digo de esas otras circunstancias de que

convenio que han firmado según disposiciones presupuestarias allá va

por lo tanto señor consejero en el día a día de la gestión ustedes cómo piensan mejorar

otros veranos y en otros momentos y que lejos de reducir

por lo tanto es lo que le estoy pidiendo lo que le estoy interpelando lo que quiero que me diga

la mayor parte de lo que le he dicho en la primera intervención ni siquiera estaba defendiendo mi gestión

que se viene acometiendo en los últimos años en euskadi

que es incuestionable porque usted hace referencia a los informes de ura coja todo coja todos los informes no solamente la parte de que queda pendiente por ejecutar los puntos que se

en el conjunto de las aguas en el país no sé usted me dice que me coordine

convenio o a firmar no todavía lo firmaré con el alcalde

de forma planificada pues tienes que intentar coordinarte con quién pues con el resto de instituciones y lo que le

es precisamente con la diputación de álava el que marca

de aquí a futuro tanto la diputación como el gobierno vasco en lo que es

tratamiento de las aguas en álava en este caso en concreto

el ciudadano cómo puede ponerse en contacto con ura

se lo digo por si no lo sabe imagino que usted lo sabría pero el ciudadano en general cree usted que es difícil

fáciles sin complicar hay un sistema de coordinación de emergencias

y en la medida que se reciben esas llamadas

lo mejor posible lógicamente no siempre se consigue averiguar el origen de los vertidos contaminantes no siempre se consigue localizar a los responsables pero en un porcentaje alto sí es así sí es así y de hecho

desde ura se viene produciendo y yo le he dado datos que he mencionado sobre el número de expedientes número de sanciones abiertas número de expedientes sancionadores etcétera

en todo el año pasado fueron diecinueve las sanciones en base a la normativa que tenemos oscilan entre cuatrocientos y quince mil euros en función de la gravedad

en este año llevamos recaudados por sanciones cuarenta y nueve mil euros le parecerá poco no solo

estamos trabajando en una cosa que nos parece importante que es

más rápida tramitación de las sanciones porque es que lo que nos ocurre es que desde que iniciamos el expediente hasta que lo cerramos con la sanción pasan más de diez meses

hay de todo desde restaurantes talleres bodegas explotaciones ganaderas empresas industriales ayuntamientos concejos juntas administrativas

a administraciones públicas y un setenta por ciento a empresas y particulares esa política de policía también la hace ura y la hace no solamente con el particular o con la empresa o con lo hace también con las propias administraciones

incumplimientos que generan vertidos no controlados y que generan problemas en la calidad de las aguas oiga que queda mucho por hacer claro claro que queda mucho por hacer

que la calidad del agua que tenemos en euskadi a nivel de ríos a nivel de aguas subterráneas a nivel

mejore y cumpla las directivas europeas claro ya sabemos que

pero sin duda creo que vamos por el buen camino y en fin aunque usted suele ser bastante ácida en sus intervenciones le agradezco

gracias señora presidenta señor casanova la respuesta es sí estamos trabajando

como usted ha mencionado el tribunal supremo determinó nos vendió estas cuestiones recogidas en el

que no se podía limitar la implantación

por motivos exclusivamente económicos o mercantiles y que la norma solo permite introducir restricciones en este ámbito por razones justificadas de interés general entre las que están las relativas a la protección del medio ambiente o la ordenación del territorio en marzo del dieciséis la comisión de ordenación del territorio aprobó una serie de criterios interpretativos en base a esta sentencia después de que pasó por el consejo de gobierno el acuerdo de iniciar la revisión del pts el veintiocho de julio del dieciséis y adjudicó la redacción del avance y el diez de noviembre la redacción

hemos recibido ya estos documentos y en este momento estamos trabajando conjuntamente con el departamento de turismo y comercio

la tramitación pública dando audiencia y participación al resto de instituciones
y a las entidades y organismos que puedan verse afectados eskerrik asko arriola jauna

y que el conjunto de la sociedad y especialmente la comunidad del comercio que está muy preocupada

de que se están avanzando en los plazos y de que realmente se va a dar una resolución al problema

y que venga a mantener el espíritu de la anterior plan territorial sectorial adaptándolo a la normativa pero sin descafeinar de alguna forma la esencia que tenía ese plan territorial sectorial en lo referente a la implantación de nuevas superficies comerciales que era un planteamiento

es una restricción que se puede plantear con criterios legales sobre la cual hay jurisprudencia establecida que admite la legalidad de esa restricción como usted ha dicho esos criterios

que existen nos gustaría realmente que ese calendario

y escudo frente a la instalación de nuevas superficies

estaremos muy atentos porque realmente este es un tema que ya viene de muy atrás las sentencias del año dos mil quince

la disposición de avanzar en marzo de dos mil dieciséis presentamos una proposición no de ley que fue rechazada por esta cámara en la cual pretendíamos que precisamente lo que usted está haciendo hoy aquí se pusiera sobre la mesa

y se avanzara no ya un plan territorial sectorial terminado que requiere una tramitación que evidentemente es larga y farragosa pero sí una hoja de ruta hacia la elaboración de ese plan

por tanto tenemos las fechas tenemos los pasos y ahora estaremos muy atentos a que efectivamente esa nueva redacción

un simple trámite sino que realmente volvamos a tener un pts que nos sirva para blindar ante la instalación de nuevas

en principio creemos en lo que usted nos está comentado pero vamos a ser

porque también entendemos que por parte de los partidos que sustentan al gobierno se están realizando una serie de actuaciones que nos llevan a pensar que ser desconfiados es prudente como

teniendo en cuenta los precedentes que tenemos aquí son precedentes que de alguna forma

de que el tratamiento que se haga desde el punto de vista de lo que

legal claro porque si no estaríamos haciendo

de hecho usted sabe que como consecuencia de la anulación o parte del tribunal supremo de esas cuestiones recogidas

hay reclamaciones patrimoniales que están ahí pendientes

y tenemos que ser cautos me dice usted que quieren ser observadores muy rigurosos

ningún problema vamos a iniciar el proceso de participación lo vamos a empezar por los ayuntamientos y vamos a hacer también

de los sectores y colectivos interesados puedan tener opinión e intentaremos acertar además el avance se plantea de una forma abierta en el sentido de que pueda haber alternativas en base a las cuales se pueda optar

un objetivo que no tiene que ser en sí mismo una restricción porque si

económicas de grandes superficies sino lo que tenemos que cumplir ahora son las cuestiones que

y que tenemos que desarrollar en el pts que son cuestiones

al mejor aprovechamiento de los pocos espacios que tenemos en el país para el desarrollo de actividades económicas que son cuestiones como el hacer

el que evitemos el uso de vehículos privados que saturen nuestras carreteras

que sin duda valoraremos dentro de lo que es el desarrollo y el estudio del avance

teniendo en cuenta la opinión del conjunto de agentes que sin duda tiene preocupación porque acertemos
en la decisión que adoptemos por el pts eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera

está ultimando decisiones fiscales para ser un territorio más atractivo y competitivo para inversores y empresas diez de mayo la patronal vizcaína cebek pide suprimir el impuesto de patrimonio el de sociedades once de mayo usted señor azpiazu se reafirma literalmente en que los tipos de sociedades ya están bastante bajos en euskadi en comparación con los de alemania

o francia veintisiete de septiembre usted otra vez señor azpiazu afirma que existe una presión fiscal efectiva baja

de sociedades en euskadi ese mismo veintisiete de septiembre el mismo día que usted decía eso el señor rementeria defendía la necesidad

actual del veintiocho por ciento un día después el veintiocho de septiembre el señor rementeria declara que el consejero azpiazu

opinan lo mismo entonces una vez más pregunta concreta clara señor azpiazu es verdad que tal y como afirma el señor rementeria

en el seno del pnv las tres diputaciones forales y usted mismo para reducir el tipo de gravamen del impuesto de sociedades del veintiocho por ciento actual

eskerrik asko bollain jauna veo que ha seguido la hemeroteca y no sé si se ha saltado alguna referencia al respecto para que vea que el tema no es fácil

para conseguir una reforma fiscal consensuada y que nos permita cumplir con los objetivos que nos hemos preestablecido realismo estabilidad y acuerdo esos son los valores que sustentan nuestra acción de gobierno señor bollain imagino que les sonarán a todos

en diversos foros errealismoa egonkortasuna eta akordioa en este escenario

hasta el dos mil veinte que son el marco para abordar el debate

primer objetivo mantener y mejorar las políticas sociales y la calidad de los servicios públicos esenciales la salud la educación la protección social

del gasto total de gobierno y segunda también tenemos que continuar

batekin jarraitzea jarduera ekonomikoa garatzeko comprenderá usted que para las instituciones de este país son objetivos prioritarios

continúen aquí como que pueda implantarse nuevas no perdamos de vista que el desarrollo económico de euskadi es fundamental

de calidad la buena marcha de la economía permitirá a las empresas aumentar los salarios reinvertir

que nos afecta positivamente a todas las instituciones y personas en cuando al acuerdo al que usted se refiere nosotros desde el departamento de hacienda y economía aportamos una serie de medidas para incorporar al debate en relación al sistema tributario vasco enfocadas a evitar la elusión y la evasión fiscal

junto a las aportadas por las diputaciones forales conforman la propuesta que en estos momentos se está debatiendo como ustedes saben con el resto de los partidos políticos eskerrik asko

he visto que tenía usted muy bien el discurso pero la pregunta era simple no le preguntaba por los retos del gobierno sino que le preguntaba sobre si existe ya un acuerdo tal y como el señor remetería ha afirmado

en el seno del pnv las tres diputaciones y en el gobierno vasco por lo tanto voy a hablar

de todos modos a nosotros nadie nos ha llamado para hablar ya sobre la reforma fiscal por lo tanto lo que usted ha dicho no es verdad si existe una acuerdo señor azpiazu el tres de octubre idoia mendia se reafirmaba de que el pse no apuesta por bajar el tipo de impuesto de sociedades sí

entonces cómo puede decir el señor remetería que ya existe un acuerdo cómo es posible entonces que exista un acuerdo en esas instituciones para rebajar el tipo del impuesto de sociedad si su socio de gobierno

o es que su socio de gobierno no pinta nada o es que no existe ese acuerdo señor azpiazu la evolución de la recaudación del impuesto de sociedades es muy preocupante tal y como usted ha afirmado

y este año se prevé que sea un siete por ciento cuando en el estado español del total de recaudación supone un doce por ciento mientras los datos macros mejoran

en caída libre cómo es posible que haya sido usted señor azpiazu

decía mi amama que donde manda capitán no manda marinero señor azpiazu

pero no se preocupe que ante estas políticas de competir con rebajas fiscales

y la totalidad de la ciudadanía vasca nuestra reforma fiscal una reforma fiscal justa una reforma fiscal que es la que necesita la ciudadanía de euskadi que es la que necesitamos todos y todas
para garantizar los derechos sociales y servicios públicos de toda la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

le he dicho que está en manos de los partidos se está negociando no sé si a usted le han invitado o no yo soy el gobierno y ese sentido

me dice lo de perdedor y marinero mire vamos a ver yo no sé si usted tiene una propuesta que sea capaz

en las juntas generales de todos los territorios históricos fiscales si la tiene y es capaz de aprobarla entonces yo le diré que usted es un auténtico capitán

si no la tiene lo que tendría que hacer es trabajar con los demás para tratar de llegar a acuerdos y llegar al mejor acuerdo posible

le decía que la prestación de servicios públicos de calidad y el impulso de la actividad económica

y no solo quedarnos en los titulares no es un tema de titulares creo que es un tema de realidad el tiempo nominal pueda estar afectado por otras variedades intervinientes como bien sabe en

nos da el tipo efectivo podría pensarse en intentar abrir una senda de confluencia entre ambos por ejemplo yo creo que hay caminos

como le digo en estos momentos insisto el documento está siendo objeto de negociación entre los partidos y el acuerdo resultante tendrá que pasar por las juntas generales que como sabe e insisto son los competentes en la materia fiscal en cualquier caso que no le quepa duda de que este gobierno tiene muy claro las necesidades económicas y cuáles son nuestros compromisos eskerrik asko

no me gustaría resultar reiterativo en mis respuestas no

es la que usted pide no conozco la vía del señor remetería al que usted se refería en la pregunta conozco de primera de mano la propuesta que hemos hecho trabajando

y a ella me voy a referir ese documento aúna una serie de medidas que como ya le he explicado al señor bollain

algunas que aportó el gobierno vasco que pretenden evitar la evasión y la elusión fiscal

ocdk eta europak zehaztutakoak nuestro compromiso como ejecutivo

escrito en el acuerdo de gobierno y leo literalmente será dice un acuerdo

y un acuerdo que favorezca a la competitividad de las empresas errenta ertainetan eta baxuetan

hobetzea tengo la esperanza de que se pueda alcanzar

dada la importancia para todos y digo para todos de la misma y soy consciente de que la certidumbre fiscal es un activo que debemos preservar

durante estos años el acuerdo de gobierno establecía realizar

como decía con el resto de formaciones políticas reitero nuestros objetivos con las medidas planteadas

las políticas públicas definidas y que es responsabilidad de las diferentes instituciones y potenciar el desarrollo económico de nuestro país eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

señor consejero tengo que decirle que esperaba de usted algo más algo más porque me ha

bastante diferente y lo siento señor consejero usted en toda esta historia

ha sido ninguneado por su partido ha sido ninguneado por las diputaciones ha sido ninguneado por la presión de otros partidos

cuál es la situación de las cajas de caudales y por eso usted pedía una reforma fiscal y no unos retoques por eso usted pedía una reforma fiscal profunda y no

sin eso señor azpiazu y se va a quedar usted y se va a quedar toda la ciudadanía de bizkaia gipuzkoa y araba y yo insisto de verdad no sé

no sé a qué están jugando entre ustedes y el partido socialista y no sé qué papel juega el partido socialista que ha dicho que no quiere tocar el impuesto

que no conoce eso que usted conoce la propuesta de los representantes institucionales pues felicidades señor azpiazu porque esa propuesta de los representantes institucionales

en ninguna de las juntas generales de ninguno de los tres territorios y estamos a seis de octubre a seis de octubre no lo han presentado ni en álava ni en bizkaia ni en gipuzkoa en ninguno van tarde no van tarde van muy tarde muy tarde la semana que viene hay consejo vasco finanzas y usted va a estar presente allí

y todavía la reforma fiscal que ustedes tanto presentaron y antes del verano dijeron que era inminente inminente ni está ni se la espera

y usted lo sabe porque se me está riendo señor azpiazu lo sabe perfectamente se lo están poniendo encima de la mesa eso va a ser como mucho maquillaje y eso es lo que se puso el otro día encima de la mesa y eso es lo que algunos les vienen aplaudiendo un maquillaje nada más y nosotros se lo hemos dicho señor azpiazu euskal herria bildu está dispuesta a hablar

si usted defiende aquella opción que defendía de incrementar la recaudación

sin tocar a los trabajadores de este país usted tiene la mano tendida de euskal herria bildu usted y todo aquel que se quiera ir por ese camino pero evidentemente si se trata de bajar impuestos a las empresas y subírselos a los ciudadanos nosotros no vamos a estar

ya lo hemos hecho tenemos una propuesta realista y realizable presentada hecha pública estamos esperando la propuesta de los gobiernos de las tres diputaciones

patatero y estamos a seis de octubre y usted hoy me habla de certidumbre fiscal certidumbre fiscal a seis de octubre

que va a ser materialmente imposible tener aprobada ninguna reforma fiscal y eso lo siento no es certidumbre fiscal sí quieren acordar acordemos

su grupo parlamentario o usted al menos personalmente no me ningunea no esto es de agradecer yo lo que le puedo decir es

van a servir para aumentar la recaudación y para la mejora de los servicios públicos también y esto yo le puedo decir lo que no le puedo decir es si estamos yendo tarde a las juntas generales porque no es un ámbito que a mí me corresponde supongo que

yo ahí no le puedo decir mucho más de lo que ya se ha dicho le puedo decir que hemos evaluado evidentemente la reforma que se hizo en el año dos mil catorce que se ha hecho una buena evaluación con precisión y

acuerdo hemos planteado como le decía también al señor bollain

y que estas medidas en este momento se están negociando entre los partidos políticos y una vez que se acuerden se llevaran a juntas no sé si fuera de plazo o

a sus responsables y también desconozco si el partido popular ha apoyado algo porque hasta donde yo sé como consejero de hacienda y economía de momento

en las juntas y termino con los tres valores que sustentan nuestra acción y de gobierno realismo

guztioi eskerrik asko en elkarrekin podemos estamos realmente preocupadas con la situación de la administración de justicia y el acceso a la justicia de las mujeres

de que una jueza ha dirigido un escrito al tribunal superior de justicia del país vasco para informar sobre la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género

este hecho y otras informaciones recabadas nos confirman que la carga de trabajo supera los medios disponibles y esto es muy preocupante señora consejera nos preocupan aquellas mujeres que son víctimas de violencias machistas reconocidas y amparadas como víctimas de violencia de género según la ley vigente es decir las que sufren violencia por parte de parejas o ex parejas

que todavía hoy no son reconocidas como víctimas de violencia machista

para el caso de las primeras se estableció en la ley la creación de juzgados especializados los que conocemos como juzgados de violencia sobre la mujer para el caso de las segundas aquellas mujeres que son víctimas de violencias machistas por otros

los asuntos son tratados en juzgados no especializados ha aumentado el número de denuncias por violencia de género ejercida por pareja o ex pareja y también ha crecido el número de denuncias ejercida por desconocidos como por ejemplo las agresiones sexuales que se producen en las fiestas locales este aumento lo corroboran los datos del poder judicial de la ertzaintza y de la fiscalía el aumento de denuncias se puede explicar por una mayor conciencia social y porque cada vez tenemos más claro que no es no en este caso celebramos el aumento de denuncias sin embargo

concienciar también para dar la respuesta adecuada es una irresponsabilidad repito una irresponsabilidad sensibilizar y generar mecanismos para denunciar para luego no tener los medios suficientes para evitar la revictimización repito es una irresponsabilidad sensibilizar y generar mecanismos para la denuncia y luego no tener los medios suficientes

revictimización la situación de la administración de justicia debe preocuparnos y ocuparnos a todas y como es obvio muy especialmente al departamento de trabajo y justicia

comenzamos por los juzgados de violencia sobre la mujer hay un acuerdo generalizado entre agentes sociales defensoras y también expresado por agentes judiciales en relación a que los juzgados los medios y la especialización son insuficientes para el volumen de trabajo que deben absorber

primero están sobrecargados la sobrecarga genera dinámicas de trabajo que tienen como principal consecuencia que las situaciones no pueden ser atendidas con la dedicación y el debido tiempo esto aumenta el riesgo de revictimización y de que los procedimientos se realicen de manera no adecuada segundo las infraestructuras y condiciones no son adecuadas la sobrecarga también tiene consecuencias en las condiciones edilicias e infraestructuras asignadas existe saturación los espacios son escasos

lo que conlleva a situaciones no adecuadas según los estándares y recomendaciones internacionales por ejemplo tener que compartir espacios de espera entre víctima y denunciado o entre este y familiares de la víctima o cruzarse en los pasillos y lugares de paso en los numerosos casos en que la mujer tiene que acudir acompañada por niñas y niños los espacios terminan siendo totalmente inadecuados para las esperas o para preservar a niñas y niños de momentos tensos y de la escucha de testimonios que tienen un marcado contenido violento y gran carga emocional

que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas que comparecen ante ellos ya sea en calidad de víctimas

indicaba aspectos a mejorar le voy a comentar tres uno el informe indicaba que hay que mejorar las dependencias que son poco amigables dos indicaba que hay que mejorar las condiciones de tiempo espacio y dinámica de trabajo porque aumentan el riesgo de victimización

y tres indicaba que hay que mejorar la especialización del personal y servicios de apoyo de la administración de justicia le traigo un testimonio

que es bastante pequeña en la que no se pueden abrir las ventanas no hay comida no hay agua

allí esperan todas juntas durante horas cada una con su estado anímico y muchas veces con sus hijos e hijas

recibir la asistencia jurídica y tomar decisiones lo tienen que contar todo allí mismo con las otras mujeres delante con sus hijos e hijas delante a veces

se contagian de las emociones y se vienen abajo y las criaturas por allí es dantesco este testimonio señora consejera pone los pelos de punta

tercero falta de especialización en toda la administración de justicia las violencias machistas exigen una respuesta especializada también desde la administración de justicia

y prejuicios atraviesan todos los ámbitos de la sociedad incluida la justicia y son un obstáculo para el acceso a la justicia de las mujeres la aplicación de prejuicios afecta a la credibilidad de las declaraciones los argumentos y los testimonios de las mujeres como partes

señora consejera la justicia cuando es ciega al género no es justicia en euskadi en primer lugar hay un déficit de juzgados especializados

sabe cuántos juzgados especializados tenemos en euskadi cinco

sobre la mujer las funcionarias y funcionarios deben extender sus horarios para cumplir con sus cometidos son los juzgados con peores condiciones laborales

los titulares se trasladan en cuanto tienen la menor oportunidad por lo que hay un número importante del personal interino mayoritariamente mujeres un dato importante a tener en cuenta señora consejera en la administración de justicia también hay segregación horizontal en los juzgados con mejores condiciones laborales

para estos juzgados no se exige una formación previa especializada como sí se hace

aunque se supone que son especializados se producen actuaciones y sentencias claramente machistas que van en contra de todos los protocolos recomendaciones

y además tenemos todos los juzgados no especializados que están interviniendo en asuntos familiares o en violencias machistas no reconocidas por ley estamos seguras

nosotras tenemos serias dudas confiamos en la voluntad y en el compromiso de todas o casi todas y de muchas funcionarias y funcionarios y personal que trabaja

pero no vemos políticas estratégicas integrales ni especificas ni transversales que aborden todos estos aspectos a mejorar señora consejera así que en este panorama

qué medidas adoptará el departamento de trabajo y justicia visto lo que le acabo de comentar para mejorar la situación en los juzgados de violencia de género en el país vasco

mila esker presidente andrea eguerdi on guztioi señora arana realmente plantea usted un problema grave

que afecta a uno de los delitos más execrables como es la violencia sobre la mujer violencia contra la mujer el símbolo más brutal

un problema que desgraciadamente lo acabamos de sufrir con los asesinatos

quiero comenzar con un recuerdo por las víctimas como ayer se hizo en este mismo pleno y aprovecho también para mostrar mi más sentido solidaridad con los familiares y allegados de noemí

y es que el agresor comete violencia sobre la mujer porque la considera un ser despojado de los derechos mínimos

respeto y capacidad de decisión al estar ligada a la subordinación histórica de la mujer respecto al hombre la violencia de género ha sido una

no obstante en el momento actual gracias al esfuerzo de las propias mujeres y de la lucha de sus organizaciones existe en nuestra sociedad una mayor conciencia y rechazo de esta violencia en todas sus versiones algo que había sido invisible

aflora y se hace reconocible a través de los medios de comunicación de las redes y de las manifestaciones sociales podemos decir que en una sociedad

contra las mujeres la sociedad responde es por tanto una exigencia que los poderes públicos lo hagamos con firmeza y rotundidad

que los tres poderes que constituimos la base de la democracia debemos intervenir para prevenir el delito detener y condenar al delincuente y hacer todo lo posible para minimizar el sufrimiento de la víctima el marco legal que se ha aprobado es la ley orgánica uno barra dos mil cuatro de veintiocho de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género en estos momentos existe un texto consolidado

es en esta ley donde se establece entre otras cosas la creación

su organización territorial su competencia su jurisdicción las sedes y la planta de los mismos esto último quiere decir dónde cuántos y quiénes han de hacerse cargo de su funcionamiento bien señoría hasta aquí

ejecutivo y judicial permítame señora arana que me detenga ahora en el caso de la comunidad autónoma corresponde a cada uno de los poderes democráticos primero una consideración teórica que está avalada por sentencias del tribunal constitucional sentencias en las que se distingue claramente entre la administración de justicia en un sentido estricto y en un sentido amplio

estricto consistente en la función jurisdiccional

que es competencia del poder judicial y en sentido amplio entendido como administración de la administración de justicia que comprende además de ello la utilización de los medios materiales y personales necesarios la primera denominada de justicia en sentido estricto está reservada al poder judicial y se concreta en sentencias dictadas por jueces y magistrados independientes inamovibles y sometidos

el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales el consejo general del poder judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados la segunda denominada administración de la administración de justicia es la encargada de poner a disposición

los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento las comunidades autónomas con competencia en esta materia debemos dotar a juzgados y tribunales

instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan que son las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado el personal no judicial tiene una doble dependencia porque en lo funcional están

y letrados de la administración de justicia y el orgánico a lo señalado

comunidad autónoma que ostenta competencia y potestad reglamentaria reconocida en la ley orgánica del poder judicial en materia de estatuto y régimen jurídico comprendida selección formación inicial y continuada provisión de destinos ascensos situaciones administrativas

en materia de medios personales al servicio de la administración de justicia tienen en cuenta esta división entre las funciones y competencias del poder judicial

y las del gobierno vasco en este momento adjudicadas al departamento de trabajo y justicia

debe dotar a los órganos del poder judicial en nuestra comunidad autónoma de los medios materiales y personales precisos para el desarrollo de la labor judicial

desde este momento le digo que el gobierno vasco no puede entrar a establecer medidas sobre la calificación de los procedimientos judiciales el reparto de los asuntos señalamientos

no obstante señoría voy a comenzar aportando algunos datos sobre las personas que dependiendo del departamento

establece el número mínimo de los juzgados exclusivos en violencia sobre la mujer que han de crearse y en qué partidos judiciales en nuestra comunidad existen cinco dos en bilbao y uno en los partidos judiciales de vitoria donostia san sebastián y barakaldo en los otros

hay un juzgado mixto que hace funciones de juzgado de violencia sobre la mujer y hay además en bilbao

especializado en violencia sobre la mujer tengo que advertirle también

gestores tramitadores y auxiliadores estoy hablando de funcionarios que aun siendo transferidos a la administración de la comunidad autónoma mantienen el carácter de cuerpo nacional

o la creación de nuevas plazas ha de ser acordada con el ministerio de justicia dicho de otro modo tanto la relación de puestos de trabajo como la oferta de empleo público

y concretando en los dieciséis juzgados que atienden casos de violencia de género hay ciento nueve personas que prestan apoyo a la labor de los jueces

tengo que reconocerle señora arana que muchos de ellos son funcionarios interinos situación que esperamos resolver en el momento en que se convoquen y resuelvan las ofertas públicas de empleo para dos mil dieciséis y dos mil diecisiete a las que me he referido hace un momento hasta aquí en lo que se refiere una parte de lo que son obligaciones adquiridas con el poder judicial

por este gobierno vasco respecto a la provisión de los medios materiales a la administración de justicia aparte de los medios comunes como son las dotaciones de espacio físico mobiliario y equipos informáticos etcétera en el caso de los juzgados de violencia sobre la mujer

cuando tomé posesión del cargo de consejera de este gobierno una de las primeras iniciativas que tomé fue la de visitar los palacios de justicia en unos casos yo misma y en otros mis colaboradoras más cercanas fruto de todas estas visitas constatamos que no había salas especiales para esperar antes de prestar

e incomprensibles toda vez que coincidían en un mismo espacio víctimas y victimarios inmediatamente solicité un análisis sobre la situación de cada uno de los juzgados

en violencia sobre la mujer como los mixtos del juzgado de lo penal de bilbao

además de nuestra responsabilidad de proveer medios materiales y personales a la administración de justicia tenemos competencias que atendemos con servicios propios como el servicio de atención a la víctima los puntos de encuentro familiar

judicial los equipos psicosociales judiciales o el instituto vasco de medicina legal todos ellos despliegan una importante labor con las víctimas de violencia de género
pero creo que tendré oportunidad de ofrecer todos los datos cuando se sustancie la comparecencia que usted misma me ha solicitado gracias eskerrik asko san josé andrea

y sabemos que son limitadas pero no entendemos la diferencia de condiciones laborales edilicias y de especialización competencias todas del gobierno vasco que existe entre los juzgados de violencia y todos los demás eso es responsabilidad suya

o los penales y no para el de las violencias de las mujeres supongo que tendrá para todos

en la primera intervención sobre la sobrecarga las denuncias aumentan según el consejo general del poder judicial en euskadi en el primer trimestre del año crecieron un ocho coma uno por ciento las denuncias por violencia machista de la pareja o ex pareja

le voy a hablar de la fiscalía según la fiscalía con la entrada en vigor de la ley orgánica uno barra dos mil quince y ley orgánica siete barra dos mil quince se ha producido un incremento en las diligencias previas y procedimientos abreviados así que continuar trabajando con los mismos medios

con ese aumento del trabajo y con los medios que ya eran insuficientes antes

mire usted señora consejera un par de observaciones sobre los juzgados de violencia sobre las mujeres la ley integral contra la violencia de género dispone que en cada partido judicial exista como mínimo un órgano judicial que asuma las competencias propias de estos juzgados

tenemos catorce partidos judiciales y cinco repito cinco juzgado especializados deberíamos de tener por lo menos

las mujeres que no tienen juzgados especializados en su territorio son atendidas por juzgados de instrucción en los que obviamente la especialización no está garantizada

cuando se solicite información sobre los juzgados de violencia sobre la mujer aparecen solo

si usted es de balmaseda por ejemplo y busca en la página web sobre el juzgado le responde no se han encontrado direcciones

la falta de información adecuada y el riesgo de ceguera de género y revictimización

se multiplican le recuerdo algo que sucedió en un juzgado especializado durante la comparecencia de una mujer en sede judicial la jueza maría del carmen molina mansilla del juzgado de violencia sobre la mujer de vitoria le preguntó de forma expresa si textualmente opuso resistencia a las agresiones y también le preguntó

cerró toda la parte de los órganos femeninos a usted esto le parece normal esto sucedió en un juzgado especializado

no me lo quiero ni imaginar que puede suceder en un juzgado con personal no especializado repito no quiero ni imaginármelo y otro dato importante la falta de formación

ni una sola formación relacionada con violencia de género ni una y en ninguno de los temas incluidos en el convenio se hace una sola mención a incorporar la perspectiva de género ni siquiera en la formación sobre derecho de familia

solo esperamos sinceramente que haya sido bastante mejor que el del dos mil dieciséis la situación de la administración de justicia es un claro ejemplo de cómo

favorable a la igualdad pero en los hechos no dedicar los recursos necesarios

cuántas mujeres decidimos no denunciar por miedo al encuentro con la justicia cuántas mujeres no están denunciando señora consejera

no pueden continuar siendo revictimizadas por la institución que tiene la responsabilidad de hacerla justicia desde elkarrekin podemos vamos a continuar trabajando en el impulso de medidas concretas para que en este panorama desolador y escalofriante que vulnera el derecho de acceso a la justicia de las mujeres mejore

que van tarde y esto es muy serio eskerrik asko arana andrea san josé andrea zurea da hitza

en la justificación de su interpelación y por el contenido de su intervención deduzco que

en un escrito que la juez sustituta del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de vitoria envió a la sala de gobierno del tribunal superior de justicia del país vasco

de nuevos casos que hay en el juzgado de violencia sobre la mujer derivados por la ertzaintza y policía local lo que provoca una excesiva carga de trabajo en el citado

la jueza elevó una propuesta a la sala de gobierno del tribunal superior de justicia del país vasco haciendo referencia a un acuerdo adoptado por la comisión provincial de la policía judicial

los señalamientos se hagan por el procedimiento de juicio rápido y no por el ordinario este escrito recibe respuesta de la sala de gobierno del tribunal superior de justicia del país vasco en la que se indica textualmente que no procede la propuesta y cito textualmente

de derivación de asuntos a juicio rápido como puede apreciar su señoría se trata de una cuestión exclusivamente relacionada con el poder judicial

no podemos adoptar medidas como usted me requiere en el texto de su interpelación en relación con el tema referido pero tenga la seguridad señora arana de que eso no quiere decir que no estemos haciendo todo lo posible por mejorar los recursos materiales y personales de todos los juzgados de nuestra comunidad autónoma como he hecho mención en mi anterior intervención separamos lo que compete a cada uno de los poderes

el departamento de trabajo y justicia pone a disposición de los juzgados concretamente de los de violencia sobre la mujer esos medios materiales y personales y además

más urgente y las medidas para solventar los problemas existentes

no es que hemos cumplido con los compromisos adquiridos y pactados en el momento de la transferencia sino que a medida que estamos implantando la nueva oficina judicial

a las personas que desempeñan labores de refuerzo puedo asegurarle que respondemos a todas las peticiones de refuerzo que nos solicitan los juzgados fiscalías y otros organismos como el instituto vasco de medicina legal en este momento tenemos cinco peticiones

de las peticiones realizadas hasta ahora en las que el motivo era la carga de trabajo derivada por casos de violencia de género tenemos nombrados cuatro refuerzos en otros tantos juzgados dos de las peticiones fueron realizadas en junio y julio del dos mil dieciséis en los juzgados de violencia sobre la mujer de donostia y de vitoria y fueron solventadas en el plazo de un mes hay un caso anterior del dos mil catorce en el juzgado y que fue debidamente atendida aclararle que este juzgado de azpeitia no es exclusivo en violencia sobre la mujer pero sí que atiende casos de esta tipología

número seis de bilbao de lo penal especializado en violencia sobre la mujer y quebrantamientos de condena cuyo refuerzo ya está nombrado también puedo decirle que dada nuestra especial sensibilidad sobre este tema cualquier baja es inmediatamente cubierta sin esperar a los plazos contemplados para finalizar

sino que hacemos esfuerzos complementarios para incidir en la eliminación de esta lacra social que es la violencia de género

es imprescindible la conjunción de esfuerzos por parte de todas las instituciones y la complicidad del conjunto de la sociedad civil el problema lo requiere

se refiere estamos dotando de los medios materiales personales estamos formando al personal

de las personas con trastornos mentales por las repercusiones que esta situación puede acarrear en sus vidas diarias

con enfermedad mental y a seguir apoyando el empleo de las personas con enfermedad mental mediante medidas de acción positiva para este colectivo bost el parlamento vasco muestra su especial preocupación por las mujeres con enfermedad mental que sufren violencia de género

dando la respuesta adecuada a sus necesidades sei eusko legebiltzarrak konpromisoa hartu